legebiltzarkideok egun on guztioi el proyecto de ley que se somete a la consideración de este pleno tiene por objeto crear un nuevo ente público denominado aukerak

euskadiko espetxeetan dauden pertsonen gizarteratzea erraztea aukerak se crea bajo la forma jurídica de los entes públicos de derecho privado

su finalidad es facilitar la inclusión sociolaboral de las personas internas en centros penitenciarios de euskadi

explicativa de este proyecto de ley voy a tratar de responder a tres preguntas la primera por qué crear una entidad pública diferenciada de la administración general

y la tercera por qué la necesidad de aprobar una ley con tanta urgencia

cuestión por qué crear una entidad pública diferenciada de la administración general hay razones de eficiencia y eficacia en la gestión pero la más decisiva tiene que ver con la legislación penitenciaria para reconocer el trabajo productivo de las personas internas dada su especial relación laboral

la actual legislación exige que la empleadora sea una entidad pública diferenciada de la administración penitenciaria

trabajo penitenciario y formación para el empleo en cataluña funciona también el llamado

una parte de estos talleres productivos se ocupan de encargos de la propia administración penitenciaria en actividades básicas para el funcionamiento cotidiano de los centros

otros talleres surgen de acuerdos de colaboración con diferentes empresas privadas en euskadi contamos con unas trescientos cincuenta personas trabajadoras reclusas

doscientos cuarenta son personas trabajadoras de talleres productivos propios y ciento catorce de talleres gestionados en colaboración con empresas externas les animo a poder conocer más de cerca esta fructífera realidad y que confiamos en impulsar y reforzar en los próximos años

el trabajo que desarrollan ya estos centenares de personas no sería legalmente considerado como relación laboral

en un mero trabajo ocupacional sin derecho a retribución ni de cotización a la seguridad social no contar con una agencia como aukerak supondría un retroceso

y además no ponerla en marcha de forma inmediata podría tener consecuencias en la futura continuidad de estos talleres productivos

en régimen colaborativo con empresas externas sería probable que en caso de interrumpirse no se retomase por pérdida de interés de las entidades colaboradoras por lo tanto resulta imprescindible crear un ente con personalidad jurídica propia para dar continuidad al trabajo productivo penitenciario en subrogación

esta consideración en cuenta pese a que el traspaso es efectivo el uno de octubre la entidad estatal se ha comprometido a seguir gestionando los talleres productivos hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno la negociación contempló este periodo transitorio para dar tiempo a la creación de aukerak segundo por qué un ente público de derecho privado porque es la figura que mejor encaja atendiendo a su finalidad y funciones

esta es la forma jurídica propia de las entidades públicas que realizan actividades productivas e industriales mercantiles y de comercialización

o servicios realizados esta figura jurídica encaja con las funciones encomendadas aukerak y es que como les señalaba aukerak se dedicará a la creación y gestión de talleres productivos industriales que dan empleo a las personas reclusas

relaciones con empresas colaboradoras para la comercialización de tales productos otros entes públicos vascos tienen esta misma forma jurídica cabe citar lankidetza nuestra agencia de cooperación para el desarrollo

el eve e i te be el instituto vasco de finanzas unibasq

potestades administrativas resultándole de aplicación lo dispuesto en la regulación presupuestaria patrimonial contratación pública de control económico etcétera aukerak asumirá dentro de las directrices que marque la administración penitenciaria vasca

y a su formación e inserción sociolaboral por tanto tendrá la responsabilidad sobre todo lo que hasta la fecha era gestionado por la entidad estatal

dentro de la resocialización a la que se orienta a la pena esta orientación resocializadora viene marcada tanto por la constitución como por la legislación penitenciaria y normas internacionales como pueden ser las reglas nelson mandela

o las reglas penitenciarias europeas dar a estas personas la oportunidad de desarrollar sus habilidades profesionales su formación y su experiencia laboral favorece los procesos de resocialización esta oportunidad mejora su autoestima

de encontrar un empleo remunerado una vez puestas en libertad y está constatado que

disminuyen la reincidencia conforme a las normas señaladas este trabajo debe ser facilitado por la administración y no supeditarse al logro de intereses económicos

organizar el trabajo productivo en los centros penitenciarios y su retribución gestionando talleres productivos explotaciones agrícolas así como los servicios auxiliares

también realizar actividades industriales comerciales o análogas y en general cuantas operaciones se realicen con el trabajo penitenciario o se les encomienden por las administraciones públicas para el cumplimiento de los fines que le son propios

y por último promover la orientación para el empleo en la última fase de la condena o en el régimen de semilibertad

en la continuidad del itinerario de inserción sociolaboral de dichas personas aukerak baliabide malgua da esku hartze integralerako

erregimenean aukerak se configura como un medio instrumental

y versátil aukerak contará con un modelo de intervención integral aukerak tendrá por objetivo facilitar segundas oportunidades a las personas

e inserción sociolaboral el modelo de aukerak no está basado en la mera ocupación de un alto el cumplimiento de la pena

definirá itinerarios de integración sociolaboral atendiendo a las habilidades y vocación de cada persona el modelo de aukerak que atenderá a la perspectiva de género la integración de políticas públicas y la inclusión en el ámbito comunitario y el modelo de aukerak proporcionará orientación acompañamiento socio laboral en la última fase de la condena o en el régimen de semilibertad

y con la red existente del tercer sector para las personas reclusas la propia denominación de aukerak oportunidades

quiere expresar que el trabajo y la formación y orientación sociolaboral ofrecen oportunidades para prepararse

quiere dotar de herramientas a las personas penadas para que provoquen pequeños cambios que repercutan en su transformación y en la sociedad en forma recíproca

aukerak quiere contribuir a lograr una sociedad mejor contribuyendo a la prevención social en cuanto a su organización

a través de la viceconsejería competente en materia de ejecución de la legislación penitenciaria en la actualidad la viceconsejería de justicia

y la presidencia del consejo el consejo de administración al que corresponde la estrategia y el control de la entidad y la dirección

la que le corresponde la gestión ordinaria y tiene la consideración de alto cargo con rango de director la ley

pública los puestos de trabajo de aukerak serán de funcionarias y funcionarios públicos o laborales dependiendo de sus funciones

es decir se reserva al funcionariado los puestos que comporten ejercicio de potestades públicas o salvaguarda de intereses generales el personal de la entidad estatal trabajo penitenciario y formación para el empleo transferido a euskadi

y sus puestos seguirán ubicados en los centros penitenciarios en concreto diez puestos de trabajo aukerak contará como recursos económicos con la dotación inicial del ente y las asignaciones en los presupuestos generales aukerak podrá contar además con subvenciones y aportaciones de otras instituciones

y otros ingresos públicos o privados en el ejercicio de sus funciones en los planes de gestión de la entidad se programarán las necesidades de financiación a medio plazo

se contengan en los presupuestos de los encargos que sobre todo la administración penitenciaria le realicé para la gestión de talleres productivos

estos ingresos por actividad formativa entendemos que podrán proceder de lanbide a través de encargos de gestión o del fondo social europeo

ajenas para la gestión de talleres productivos de todas formas en esta actividad en ningún caso podrá actuar bajo criterios de maximizar el beneficio

el régimen económico patrimonial de contratación presupuestario financiero y de control económico y contable será el propio de las entidades públicas de esta naturaleza

y el sector público dependiente o vinculado a ellas y en cualquier caso esta futura consideración deberá remitirse a los términos que expresen los estatutos de la agencia

y ya por último la tercera pregunta por qué la necesidad de aprobarla

tanta urgencia porque la creación de un ente público de la administración institucional requiere de una ley formal y porque existen razones

para poner en funcionamiento aukerak antes del treinta y uno de diciembre y es que contar con un ente de estas características es la condición necesaria para poder asumir la gestión de los talleres productivos penitenciarios y dar continuidad a las relaciones laborales especiales de más de trescientos cincuenta personas reclusas

y de las cotizaciones a la seguridad social por esta razón inmediatamente al cierre del traspaso se ha elaborado y tramitado el anteproyecto de ley por el procedimiento de urgencia

del artículo ciento sesenta y tres del reglamento del parlamento vasco

la lectura única es razonable dada la extraordinaria y urgente necesidad de la aprobación de esta norma y dada la extrema sencillez del proyecto de ley

finalidad funciones y naturaleza de ente público de derecho privado siendo el resto de los apartados una mera remisión a la regulación común a los entes de tal naturaleza y por otro lado porque el proyecto de ley no afecta al ordenamiento de las instituciones de la comunidad autónoma

tximeletak bezala eraldaketa global bat sortuz si tienen a bien apoyar este proyecto de ley habremos dado un paso más para asentar las bases del modelo penitenciario en euskadi que se inspiran en las resoluciones aprobadas por el pleno del parlamento vasco en fecha trece de marzo del dos mil diecinueve

es uno de los factores más importantes para la resocialización y la no reincidencia por eso espero que se apruebe con el máximo consenso posible este proyecto de ley

la creación de aukerak es una palanca para que permita esos pequeños cambios

legebiltzarkideok egun on guztioi los socialistas vascos vamos a respaldar con nuestros votos el proyecto de ley de creación de aukerak agencia vasca de reinserción social

igualdad justicia y políticas sociales la señora artolazabal

aprobado por acuerdo de consejo de gobierno de diez de noviembre de dos mil veinte lo cual es lógico teniendo en cuenta que la creación de aukerak emana del reciente acuerdo de traspaso de funciones y servicios de la administración del estado a la comunidad autónoma del país vasco en materia penitenciaria

para mejorar el autogobierno desde el respeto a las leyes y a la seguridad jurídica el traspaso efectivo de tales funciones se realiza mañana primero de octubre y conforme a dicho acuerdo la entidad estatal trabajo penitenciario y formación para el empleo

con el fin de dar continuidad a los talleres por ella gestionadas en tanto se cree su equivalente autonómico

principio esencial de toda organización política en cuanto a esta corresponde la determinación de las concretas formas de organización y personificación a través de las cuales se trata de lograr la mejor y más efectiva consecución de los intereses generales cuya satisfacción tiene encomendados

que da respuesta a la obligación de dar trabajo a los penados en los establecimientos penitenciarios vascos

que recoge fundamentalmente las resoluciones parlamentarias sobre el modelo penitenciario que salieron del pleno monográfico de esta cámara de trece de marzo de dos mil diecinueve

euskadi elaborado por un equipo multidisciplinar de expertos liderados por los entonces viceconsejeros de justicia y socialistas miren gallástegui y mikel unzalu

detallada la sailburu pero sí me gustaría incidir en la necesidad y urgencia para la creación de la agencia vasca de reinserción social aukerak como ente público diferenciado con el fin de acometer como empleador todo lo referente al trabajo la formación ocupacional

y debe hacerse con la antelación suficiente teniendo en cuenta los plazos señalados a fin de garantizar la continuidad de las relaciones laborales de las personas trabajadoras internas

a la seguridad social en definitiva se dispone de aquí al uno de enero de dos mil veintidós tanto para crear y regular la entidad pública como para ponerla en marcha

la gestión de los talleres en producción y la condición de empleadora de más de trescientos cincuenta personas trabajadoras internas en centros penitenciarios retribuirles sus

flexible y versátil encaminado a través de un modelo de intervención integral a facilitar segundas oportunidades a las personas privadas de libertad

sino definiendo itinerarios de integración sociolaboral atendiendo a las habilidades y vocación de cada persona

dimensión última que incluye proporcionar orientación y acompañamiento sociolaboral en la última fase de la condena o en el régimen

y el engarce con otros servicios públicos singularmente lanbide y con la red existente del tercer sector para las personas

existen numerosos estudios que confirman que la reinserción social está directamente vinculada a la reincorporación al mercado de trabajo una vez cumplida la pena

el artículo veinticinco apartado dos de la constitución española

proscribe las penas de trabajos forzados reconoce el derecho al trabajo remunerado y a los beneficios de la seguridad social de las personas penadas como decía esta orientación resocializadora viene marcado tanto por la constitución como por la legislación penitenciaria y normas internacionales como las reglas nelson mandela de las naciones unidas para el tratamiento de las personas reclusas o las reglas penitenciarias europeas

puesto que se trata de gestionar actividades industriales o comerciales en el mercado y resulta la única forma posible de dar continuidad a las relaciones laborales especiales de las personas

que pasará a prestar sus servicios en aukerak agradecerles su trabajo que estoy convencida de que es vocacional en pro de la reeducación y reinserción social de las personas condenadas a penas privativas de libertad

cuente con el apoyo del resto de los grupos de esta cámara por su urgencia necesidad oportunidad conveniencia por razones de eficacia y eficiencia en la gestión pero sobre todo para cumplir la legislación penitenciaria vigente sailburu artolazabal como ha dicho la creación de aukerak no es un punto de llegada sino un punto de partida tienen usted y su equipo

a poder ejercer un trabajo remunerado a obtener los beneficios correspondientes de la seguridad social así como al acceso a la formación

y todo ello con el fin primordial de aumentar sus posibilidades de encontrar un empleo remunerado

y reincorporación a una vida plena una vez cumplida la condena espiritu horrekin berreziketarekin eta

por desarrollar y trabajar en pos de un modelo penitenciario en el que se logre la reinserción a través de la reeducación la formación la obtención de una experiencia laboral contando siempre con las inquietudes de cada persona

para nosotras no es una opción que alcanzar la rehabilitación

dependa de oportunidades extraordinarias como tampoco lo es que como sociedad

por conceptos opuestos a la reinserción la restauración y la igualdad como pueden ser el odio la venganza o la falta de confianza

el derecho a segundas oportunidades para quien habiendo cometido un error y cumpliendo con las condiciones establecidas pueda rehacer

y aquí entra en juego aukerak de momento decir que su nombre ya es toda una declaración de intenciones la agencia vasca de reinserción social

y versátil encaminado a través de un modelo de intervención integral

pero que es importante recalcar a facilitar segundas oportunidades

por medio de la formación el desarrollo personal y la inserción laboral un modelo no basado

sino como también se ha dicho definiendo itinerarios de integración socio laboral

que el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos solo cabe una corrección presos

vio conmutada su pena a cambio de pasar cinco años de trabajos forzados en un campo de concentración

una lección positiva que todos debemos aplicar y en este momento euskadi apuesta por aplicar toda persona puede cambiar

en la vida y en la sociedad pero para darse cuenta de ello tuvo que pasar cinco largos años de su vida privado de libertad en un lugar

donde incluso dos siglos después faltan en muchas ocasiones las oportunidades abunda la estigmatización y escasea la generosidad para poder entender que todos y todas tenemos derecho a una segunda oportunidad sin olvidar que en algunas ocasiones

ni siquiera han tenido una primera y en esa idea la de apostar por las segundas oportunidades es en la que en euskadi es la que queremos la que entendemos y la que vamos a llevar por bandera pero volviendo al terreno de la gestión

las relaciones laborales de los penados tienen un carácter especial y ello exige la creación de entidades públicas diferenciadas que sean las que

y que a su vez operen en el mercado en actividades productivas industriales mercantiles y de comercialización de los productos o servicios prestados y por ello aukerak se constituye como un ente público de derecho privado adscrito al departamento competente y que a partir del día treinta y uno de diciembre se subrogará en el papel que hasta ahora desarrolla la entidad estatal trabajo penitenciario y formación para el empleo siendo su equivalente

ante una excepción a lo dispuesto en el decreto ciento sesenta y nueve barra dos mil veintiuno de seis de julio que aprueba el acuerdo de la comisión mixta de transferencias estado

y que materializa el traspaso a nuestra comunidad autónoma de las funciones y servicios sobre ejecución de la legislación del estado en materia penitenciaria

tiene fecha uno de octubre de dos mil veintiuno y dicha excepción se debe exclusivamente a que ante todo debe darse seguridad y garantías a las personas privadas de libertad en el aspecto

se debe garantizar la continuidad de las relaciones laborales de las personas trabajadoras internas en un centro penitenciario sin perder ni un ápice

ni de sus cotizaciones a la seguridad social por ello la creación y puesta en marcha de aukerak debe realizarse con una antelación suficiente

como ha expuesto la sailburu de ahí la justificación a la tramitación de este proyecto de ley simple y sencillo pero eficiente y eficaz imprescindible mejor dicho por el trámite de procedimiento de lectura única para asegurar que como ente público diferenciado pueda acometer desde el día uno de enero de dos mil veintidós sus funciones de empleador en todo lo referente al trabajo a la formación ocupacional a la inserción sociolaboral de las personas condenadas a penas privativas de libertad con toda la seguridad jurídica que la materia requiere

de derecho público porque sus actividades incluyen la creación y gestión de talleres productivos que dan empleo a personas internas lo que implica realizar actividades productivas industriales mercantiles y de comercialización como ya se ha dicho de los productos y servicios realizados

conforme al derecho privado pero ello sin perjuicio de que en el ejercicio de potestades públicas actúe conforme al derecho público

encaja más apropiadamente en la figura de los entes públicos de derecho privado y no así en otras opciones como la creación de un organismo autónomo sociedad pública bukatzeko no me gustaría terminar sin hacer una referencia y asimismo bueno aplaudir el ejemplo dado por maixabel lasa ahora de actualidad por una cinta de reciente estreno con su alegato por la concordia el arrepentimiento y la capacidad de perdón precisamente en dicha cinta se insiste en la necesidad de diálogo y en poner sobre la mesa el valor de los encuentros restaurativos pero para que el modelo funcione las tres patas deben estar de pie y coordinadas la población reclusa

en centros penitenciarios y la sociedad civil si algo falla el modelo no funcionará y el discurso

en buenas pero meras palabras y para ello aukerak será el instrumento con el que se va a trabajar activamente para que estas tres patas

herramientas que faciliten su formación e inserción laboral

implicada y dispuesta a dar esas segundas oportunidades aukerak gure eredua da eta ez du oinarri

sinesten duen eredua orduan y por ello desde el grupo de euzko abertzaleak vamos a votar a favor del proyecto de ley que nos ha presentado en este pleno

solicitar también el apoyo al mismo por parte de todos los demás grupos por ser un instrumento necesario fundamental para el desarrollo de nuestro modelo penitenciario el modelo penitenciario de euskadi en el que evidentemente

tienen todo nuestro apoyo eskerrik asko guztioi eskerrik asko

gracias señora presidenta buenos días lehendakari consejeros señorías en poco más de doce horas la gestión de las prisiones pasará a manos del gobierno vasco muchos años después de plantearse y ahora que se trata de excarcelar de conceder beneficios penitenciarios de reintegrar en la sociedad y no de encarcelar hablemos de esta agencia vasca de reinserción social a la que han bautizado como oportunidades

de ahí que se apresuraran a encontrarse con direcciones de cárceles vascas para allanar el camino a su gente a nadie le sorprende si afirmo que vox está radicalmente en contra de esta transferencia que defiende además la gestión de las prisiones

y por pura coherencia no podemos respaldar la creación de una nueva agencia vasca una agencia vasca que además presenta muchísimas holguras

trabajo penitenciario y formación para el empleo la que como consecuencia de la transferencia que será efectiva mañana será sustituida por aukerak el próximo día uno de enero los objetivos que nos presenta la sailburu son razonables al menos sobre el papel la formación de la población reclusa para el empleo la creación de itinerarios para su integración sociolaboral

públicos y con el tercer sector para actuar ya en el que será su entorno social

en la forma de hacer todo esto están en la decisión relativa de a quién sí y a quién no

y esto nos vuelve a llevar a los presos de eta a terroristas que siguen sin arrepentirse del daño causado

y que insisten en no colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para el esclarecimiento de cientos de crímenes sin resolver yo no imagino a la señora artolazabal a la postre presidenta de aukerak defendiendo tratar a un pederasta o a un violador como a cualquier otro preso

estoy segura de que ni se le pasaría por la cabeza más aún si se tratara de delincuentes reincidentes orgullosos de sus delitos

muestra a las claras en el escenario en el que nos movemos vox no cree en la reintegración social de quien aún justifica haber desintegrado vidas y familias

personas a las que en muchos casos se les niega el derecho al duelo

por qué en este punto me voy a hacer eco de algo que la propia consejera dijo

ninguna política es necesario aclarar que lo que hicieron apoyaron no condenaron e incluso legitimaron no tuvo sentido estuvo mal y fue

no lo olvidemos no es otro es justo ese nulo arrepentimiento nula colaboración y permanente justificación las palabras vacías políticamente correctas sujetas a la nueva moral progresista de poco sirven en la calle cuando bajamos al suelo el camino hacia el infierno está pavimentando de buenas intenciones de buenas palabras

pero la prudencia aconseja evitar riesgos como la justicia y la razón

y en su modelo penitenciario las referencias a las víctimas de delitos son escasas muy escasas sin duda este va a ser un caballo de batalla en la gestión del día a día a la hora de conceder privilegios y beneficios penitenciarios un papelón además muy comprometido para quienes están llamados a dirigir la agencia aukerak presididos por la consejera artolazabal y entre seis y nueve personas más

por qué no sabemos nada del perfil de estas personas cuando ya todo está medio gestionado sí se asegura en su proyecto de ley que las reglas de funcionamiento de la agencia se establezcan vía decreto del gobierno vasco y todo suena a una nueva entidad para mayor gloria de fieles con carnet

afines a manejo y control de la agencia por parte del principal partido del ejecutivo vasco con absoluto oscurantismo y opacidad la experiencia eso es lo que nos dice es su lastre es lo que llevan haciendo con gran tenacidad desde hace ya décadas

gestión de prisiones centralizada ni un solo privilegio ni beneficio penitenciario para presos que no se arrepienten de los delitos cometidos

no a una nueva entidad manejado a su antojo por el pnv

como puede comprobar razones más que de sobra para votar que no a este proyecto de ley que hoy se nos presenta muchas gracias eskerrik asko martínez andrea

muchas gracias señora presidenta señorías se nos plantea hoy aquí

un proyecto de ley para la aprobación de una entidad como se ha dicho un ente público de derecho privado

proyecto de ley que viene además por el procedimiento de lectura única procedimiento de lectura única que sustrae cualquier tipo de posibilidad de este parlamento a los grupos de suscitar un debate en mayor profundidad

enmiendas repensar algunas cuestiones y sobre todo el papel de este parlamento como órgano de control del gobierno nosotros vamos a votar que no a este proyecto de ley

por razones de forma y de fondo por supuesto que nosotros estamos a favor como no podía ser de otra manera de que existan procesos de entidades que garanticen la reinserción social de las personas presas está en el artículo veinticinco de la constitución

las cuestiones relativas a los trabajos que realizan las personas presas dentro

lo que pasa es que nosotros creemos que esta era una ley suficientemente importante como para que hubiese tenido una tramitación parlamentaria ordinaria y si no ordinaria por la prisa por los plazos como

para que este parlamento tenga una mínima oportunidad de pronunciarse sobre algunas cuestiones aquí hay grupos que difieren en el planteamiento de esta cuestión pues como la noche y el día el norte y el sur pero por lo menos que exista un debate público y que exista un debate en este parlamento sobre esta cuestión yo voy a ir respondiendo a las preguntas que se planteaba la consejera también en tercera persona

esta transferencia en general la de las prisiones ha sido una transferencia gestionada en mi opinión con mucha prisa mucha prisa

quizá por parte de los dos ejecutivos también el central y el autonómico y sobre todo con cierta falta de información a este parlamento yo no digo que no sea necesario suscitar aquí este debate y bueno ver de qué manera lógicamente se va a gestionar esta parte tan importante del proceso de reinserción social

por qué nos oponemos nosotros por cuestiones de forma en primer lugar porque el gobierno ha alegado circunstancias extraordinarias extraordinario no es sinónimo de tener poco tiempo esto es algo que los ejecutivos nacionales el último sobre todo el que está ahora mismo presidiendo el país españa utiliza mucho los decretos leyes no hay un montón de decretos leyes que se aprueban alegando no es que tenemos prisa

y parece que el gobierno vasco se ha contagiado también de esa cuestión extraordinario no es sinónimo de que haya poco tiempo es que casi vamos de mal en peor con la ley al final llamada ley antipandemia y tal que se presentó como una proposición de ley

eso ya fue en mi opinión una bofetada a este parlamento pero traer una ley ya

sobre todo en estas condiciones que desarrollaré a continuación pues creo que realmente

los sistemas también de control y sobre todo el sistema parlamentario en sí mismo vamos a ver

con procedimiento de lectura única consiste en que la transferencia va a entrar en vigor este viernes este uno de octubre y que bueno hay un acuerdo con el

que gestiona estas cuestiones relativas a los pagos de los salarios y la seguridad social de las personas presas

para permitir que la comunidad autónoma en este caso realice los ajustes internos que lógicamente son necesarios oiga y por qué hasta el treinta y uno de diciembre y no han negociado con el gobierno central seis meses más

seis meses más que dé tiempo a traer a este parlamento por lo menos por lo menos una ley por el procedimiento de urgencia seis meses más

en segundo lugar es que es bastante posible que

así lo va a establecer pero es que si se han leído señorías el proyecto de ley que entiendo que lo han hecho todos verán que hay una cláusula al final de las disposiciones adicionales que dice bueno

porque en realidad esta ley lo que dice se creará una agencia que luego su regulación estará en unos estatutos

por si no diera tiempo a hacer todo esto y por tanto la agencia no puede entrar a funcionar el uno de enero de dos mil veintidós

ejercerá estas funciones mientras tanto o sea ya la propia consejería el propio gobierno se da cuenta de que esto va a ser complicado hacer todo esto

por eso digo yo por qué no se ha negociado un tiempo adicional en cuanto al texto en sí mismo extraordinario y urgente no es tampoco sinónimo de simplicidad o de

un poco más trabajado esto no lo digo yo eh esto lo dicen sobre todos los informes de la cojua

que contiene frases que son lapidarias es decir aquí se habla por ser diplomáticos jurídicamente hablando de la escasa densidad de regulación

crear aquí una entidad que está bien opte usted por como ha dicho la consejera por un ente público de derecho privado que es la forma más versátil de gestionar esto vale de acuerdo ningún problema

la razón de hacer esto por ley no es simplemente el acto formal de venir a hacer esto por ley es que la ley contenga lo que se denomina un contenido mínimo esencial un contenido básico

a partir del cual luego los estatutos efectivamente lo pueden regular y la cojua lo ha establecido así no hay más que leerse el informe con tranquilidad y ahí aparece la escasa densidad la escasa densidad normativa que ha sido fina en este caso la cojua ha sido muy amable con los servicios de la señora consejera pero lo dice

la oficina de control económico también les da un pequeño aviso oiga es que ustedes tenían que haber previsto también el plan de actuación

por eso nosotros pensamos que una cuestión tan importante

a veces se nos dice no es un tema técnico simplemente para pagar los salarios otras veces no va a ser la columna vertebral de todo el sistema en euskadi bueno oiga pues

que insisto está en el artículo veinticinco de la constitución y que es algo en lo que existe un amplísimo consenso social y político ahí yo creo que no hay fisuras esta remisión que hace la ley en la que prácticamente se dice se crea este órgano y luego esto se va a regular a través de los estatutos

pero aquí lo que vamos a aprobar hoy señorías lo que se va a aprobar con los votos de la mayoría es una delegación legislativa en blanco que se le va a autorizar al gobierno a que haga lo que considere constituya la agencia esta como estime conveniente aquí me pueden decir

sí es una entidad técnica que simplemente va a pagar salarios va a gestionar la seguridad social

una cuestión por qué no se ha hecho un convenio con el estado para gestionar esto

en cualquier estado descentralizado que es una oportunidad ideal para establecer convenios de colaboración entre distintas administraciones públicas si es verdad que es una agencia

y ya con el ámbito de la competencia que tenga asumida la comunidad autónoma del país vasco pues desarrolle los protocolos como estime conveniente los procesos los itinerarios lo que estime conveniente y que luego la ejecución

una entidad adicional qué aporta esta entidad adicional aporta algo hay algún valor añadido en esta entidad adicional

a la dotación actual que es aproximadamente unos once funcionarios transferidos pero está previsto que eso sí la plantilla total va a ser en torno a treinta y nueve personas

y una serie de dotaciones más cómo van a ser los procesos de contratación de estas personas porque claro tanta prisa tanta prisa parece ser que el uno de enero va a tener que estar toda esta gente también trabajando

el proyecto de ley mejor dicho tampoco lo dice por todas estas cuestiones señorías yo creo que el parlamento ciertamente debería votar en sentido contrario

un proyecto de ley pero que cubra esta serie de cuestiones

de urgencia lo ideal en mi opinión es que se hiciera un convenio con el estado

habitualmente la consejera de autogobierno eso sería eficiencia no duplicar estructuras de manera inútil eso en mi opinión sería en opinión de nuestro grupo sería lo ideal que no

y así se pueden introducir enmiendas se puede llegar a un cierto consenso en esta cámara pero traer un proyecto de ley de lectura única tan breve que prácticamente es una remisión a que luego el gobierno

disponga la regulación hasta la última coma de esta cuestión

de la reinserción social ni mucho menos votamos en contra por las formas y luego votamos en contra porque creemos que hay otra forma de gestionar este aspecto concreto de esta competencia

volver a insistir en lo que ya ha trasladado la sailburu en este acto y es que el reglamento del parlamento vasco

ese que permite que se tramite un proyecto de ley

no se vulnera ningún tipo ni de derechos ni de controles simplemente se aplica un artículo del reglamento de este parlamento en este caso además

reiteramos la lectura única es razonable dada la necesidad

y dada además la extrema sencillez del proyecto de ley la sencillez del proyecto de ley es un texto articulado único se reduce a la creación

de reinserción social su denominación la finalidad funciones naturaleza de ente público de derecho privado siendo el resto de los apartados

de tal naturaleza es un proyecto de ley que no afecta al ordenamiento jurídico de las instituciones de nuestra comunidad autónoma

jurídico de las instituciones forales ni al régimen electoral ni tampoco a los derechos deberes y libertades de la ciudadanía

se ha expuesto dónde radica su necesidad es imprescindible garantizar que la gestión de la reinserción social la gestión de todo lo que implica los contratos la tramitación laboral y los contratos de las personas que están actualmente privadas de libertad y tienen un trabajo

así como todas las cotizaciones a la seguridad social no se vean absolutamente en nada afectadas ni un ápice de pérdida ni en derechos laborales

y efectivamente mañana como he dicho en mi intervención va a ser un día importante uno de octubre es el momento en el que fija el decreto para hacer efectiva la transmisión pero la transmisión de la organización y funcionamiento de las cárceles no

penitenciaria no nos traiga un debate que además de cansino es tergiversador hablamos de transferencia de la gestión de las prisiones y de un nuevo modelo

esa es nuestra apuesta y por eso crear aukerak porque nuestra apuesta

por la vía restaurativa la política penitenciaria que se desarrollará en euskadi ha de ser un activo para la convivencia y para la normalización política y evidentemente en ello estará aukerak

en un modelo propio el gobierno vasco ha diseñado un modelo penitenciario propio basado en las tres erres reeducación resocialización

un nuevo sistema penitenciario vasco que se asentará sobre las bases de los modelos restaurativos

en toda europa y para ello se ha fijado una fecha

o uno de enero de dos mil veintidós euskadi tiene un perfil propio de servicio público que ahora vamos a aplicar también a las políticas penitenciarias el fin único y último es que la resocialización de las personas sea una realidad y para ello se hace imprescindible crear las condiciones que lo faciliten y que lo promuevan

encargado de ello eskerrik asko eskerrik asko

gracias presidenta no iba a intervenir en la réplica seré muy breve pero

es que es distinto lo que estamos discutiendo aquí hoy totalmente distinto

no es un procedimiento habitual eso está claro y ya que estamos oiga usted que es jurista también por qué no me busca un ejemplo a nivel nacional en españa comparado en el que se cree un órgano de estas características a través de un procedimiento de lectura única hombre que el reglamento lo permite o que el reglamento al final la interpretación que se hace efectivamente lo permite bueno vale de acuerdo todavía no está

que eso es lo que le salva a este proyecto de ley el que todavía no está aprobada sector público vasco pero yo le animo

de cuándo se ha hecho esto otra vez y yo luego la otra cosa que me sorprende mucho

como si no se hubiera hecho reinserción social desde las instituciones comunes del estado o desde trabajo penitenciario no se ha hecho reinserción social hasta ahora no está haciendo reinserción social el gobierno de pedro sánchez en su opinión que yo aquí tengo mis dudas realmente no se hace y ahora

podemos adornarlo con cosas podemos utilizar una metáfora que un

en economía sobre todo una metáfora la de la mariposa

para ver cómo la casualidad no la causalidad a veces acaba afectando de manera negativa a la economía pero podemos tener este debate sobre las prisiones etcétera

desde luego el debate de aquí de hoy es aprobar a través de un procedimiento muy extraordinario que es la lectura única un cheque en blanco prácticamente para que el gobierno regule a través unos estatutos generales que veremos a ver cuándo los acaba presentando un nuevo organismo

de capital importancia me pregunto qué opinión tendría el gobierno de encontrarse en la bancada contraria extraordinario es

extraordinario es pues un problema serio que no era fácil prever

desde hace ya bastante tiempo hombre era bastante previsible cuándo iban a tener más o menos cerrada la transferencia e insisto es que no entiendo por qué no se puede

del medio propio nacional de trabajo penitenciario la gestión de esto unos meses para que en este parlamento se pueda discutir una ley al menos por el procedimiento de urgencia eso es lo que no se entiende lo otro es otra discusión aquí sobre todo es defender la posición del parlamento en un sitio donde se pueden llegar a acuerdos y sobre todo

la mejor legislación posible y desde luego esta no lo digo yo lo dice la cojua lo dice la oce no es la mejor legislación posible

horregatik ere erabaki dugu gure baiezko botoa ematea es verdad que ahora cuando empiece

atender algunos de esos retos se han señalado yo sí que quisiera también insistir en la necesidad de atender a las condiciones de trabajo

y desde luego también a la necesidad de que se vincule el trabajo con los programas de reinserción laboral que se lleven a cabo para

o incluso a segundos grados flexibles creo que

que debatir que hablar que consensuar y en este caso bai nik espero dut

a la hora de transformar el sistema carcelario hacia un sistema que asumirá como objetivo principal la reinserción de todas y cada una de las personas en ese sentido las personas en cumplimiento de una condena privativa de libertad deben tener

para poder desarrollar una vida digna por ello el hecho de la creación de aukerak agencia vasca de reinserción social y que este

aquello que tenga que ver con la reinserción para nosotras es importante y creemos que debemos estar aquí horrela argi dago espetxe transferentziak

prentsa askatasuna eta pribatutasunerako eskubidea la educación pública es la segunda competencia más importante de la administración autonómica lo es en términos presupuestarios en términos de personal y en la cantidad de personas que cada día giran en torno a ella

los dos pilares fundamentales de lo público que están en el centro de la administración y a las que este parlamento tiene

y en el fondo lo que vamos a discutir hoy tiene que ver con el blindaje con el blindaje de esta administración y de la educación pública ante la entrada en tromba

empresas y de las grandes corporaciones tecnológicas de silicon valley google amazon facebook

microsoft las grandes gigantes de internet

que debemos evitar que entren por la puerta grande las más poderosas multinacionales del planeta en la red pública

sino porque la educación pública había sido hasta ahora un muro

y les digo esto para dejar claro que este debate no es un tema menor es un debate que probablemente defina

cuál será el modelo de escuela pública en el futuro y qué tipo de administración pública tendremos y sobre todo la concepción del conocimiento y progreso

la cuestión del software propietario o privativo y el software libre no es otra

entre una concepción del conocimiento derivada de la historia del apropiacionismo ese genio emprendedor de un garaje de california y la otra que es la que nosotras defendemos que es que el conocimiento el desarrollo tecnológico el desarrollo de las fuerzas productivas

oinarria ere qué queremos ese modelo de grandes corporaciones que facturan más que el producto interior bruto de muchas naciones esas empresas que penetran en nuestras vidas tanto tanto

nuestras enfermedades tanto es así que el principal negocio de estas corporaciones no es otro que nuestros datos guk ere ez dugu nahi hori elkarrekin podemos izquierda unida quiere el otro modelo

vivo transformable el de la biblioteca universal el del sueño de un internet para todas el de un consciente colectivo

modificar y mejorar el software estas libertades combinadas son las que nos da la soberanía tecnológica y esto nos da una independencia total

alde batetik el de las famosas tic tecnologías de la información y la comunicación

el activo fundamental que es lo que he comentado antes los datos y la información bigarren honetan funtsean eta gure eskoletarako eztabaidatzen ari garena da

su privacidad en el uso de las herramientas que son hoy ya el equivalente a nuestra pizarra y nuestra tiza es un debate fundamental

a uno de los ámbitos centrales de la administración pública vasca y a uno de los ámbitos más relevantes del desarrollo social del futuro que es el desarrollo tecnológico

lo que estamos debatiendo hoy son la contraposición de dos modelos y de dos formas de entender la tecnología y el conocimiento una

y también en el gobierno vasco que es poner a disposición de google y microsoft las identidades

y depender de sus tecnologías en nuestro sistema educativo la soberanía tecnológica está totalmente entregada a capitales privados

aunque no podemos llegar a contar con un hardware libre sí que es posible entre equipamientos con diferentes niveles de dependencia bueno pues aquí en el sistema educativo se ha elegido el equipamiento más dependiente esto nos ha llevado

que en diez años se han quedado obsoletos y así qué pasa que la administración se ve abocada a renovar estos dispositivos aunque se encuentren en buen estado

porque no se puede continuar con su uso esto contraviene

asuntos que aquí hablamos muchas veces la sostenibilidad y los principios de economía circular que se supone que estamos promoviendo desde hace tiempo están en la agenda

de nuestros hijos e hijas de nuestras estudiantes a ese sistema que monetiza sus datos sus documentos sus trabajos de clase la planificación docente

proposatutako eh bildurekin adostutako erdibideko zuzenketan por un lado en la transacción a la que hemos llegado

brindamos a los niños y niñas al profesorado y también a las familias la capacidad de desarrollar soluciones propias a sus propios problemas

para mejorar su propio sistema sus propias necesidades y además estamos dando herramientas que les acercan al trabajo cooperativo y colaborativo y a un sistema de gobierno mucho más democrático por otro lado también hay que trabajar con el

hasta la robótica y también la migración

que está recogido en nuestra enmienda esto tiene una serie de impactos directos en muchos sectores pero el que más claro podemos ver es que se puede crear empleo de calidad

para las arcas públicas no dependiendo de pagar miles de licencias de uso beraz

acabo con lo que decía diana franco representante del colectivo hezkuntzan

en la propuesta concreta de bildu sobre el software libre

porque la verdad es que en este asunto no partimos de cero hace ya casi una década en julio del dos mil doce en concreto

de apertura de software que básicamente permitía poner a disposición de otros usuarios las aplicaciones informáticas desarrolladas a partir de ese momento

que se desarrollasen a partir de ese momento debieran de ser en código abierto y por tanto reutilizables para elaborar ese decreto al que hago referencia el gobierno vasco de entonces contó con interlocutores como el clúster cic de euskadi gaia y la asociación de empresas de software libre de euskadi esle el consejo de gobierno

que permitía a las administraciones públicas vascas poner a disposición de otros usuarios las aplicaciones informáticas desarrolladas por sí o por medio de terceros de este modo euskadi se situaba a la cabeza en el desarrollo del software libre estableciendo el principio general de apertura

de la administración electrónica sino de cualquier aplicación informática propiedad de la administración vasca en aquel momento hasta ese momento las aplicaciones informáticas desarrolladas por cualquier entidad en general solo eran conocidas y estaban a disposición de su propietario viéndose muy restringidas las posibilidades de que fueran reutilizadas por otros a partir de ese momento se cambia el paradigma pues todas las aplicaciones serían abiertas

a no ser que concurriesen condiciones relacionadas con la seguridad o que interfiriesen con acuerdos de colaboración entre el sector público y privado con la aprobación de este decreto se aplicaba a la informática las tres erres

primero reducir el número de aplicaciones similares segundo reutilizar aplicaciones informáticas o componentes de ellas y tercero reciclar dichos componentes para crear aplicaciones para otros fines o incluso para otros sectores económicos al mismo tiempo la administración vasca ahondaba en su determinación

al obligarse a reutilizar lo ya existente con el objetivo de reducir los costes asociados y de que dichos recursos pudieran utilizarse en procesos que aportaran

el decreto no solo favorecía y fomentaba la competitividad la calidad y la eficiencia de quienes desarrollasen aplicaciones informáticas para el sector público

haría posible que se pudiesen desarrollar nuevos productos

que diez de las diecisiete comunidades autónomas españolas utilizan software de código abierto o herramientas basadas en él el país vasco en aquel momento

se convirtió en la primera administración de españa y de europa en regular a ese nivel la contratación de software público con la aprobación del decreto de reutilización del software en dos mil doce desgraciadamente hay que lamentar que a fecha de hoy existe

por lo que hay que avanzar en ese camino y especialmente en la alfabetización digital

fortaleciendo la capacitación del profesorado y del alumnado contando con las infraestructuras y herramientas facilitadoras de un proceso formativo de calidad

e igualdad de oportunidades en el ámbito de la tecnología y apostar por las soluciones y plataformas tecnológicas que la mayoría de los centros educativos demandan

que el sistema educativo requiere nos hubiera gustado que se hubiera podido alcanzar una transacción con la propuesta original presentada por bildu

de forma adecuada nuestra enmienda no habiendo sido posible dicho acuerdo mantenemos
que hemos presentado los socialistas vascos junto con los nacionalistas vascos muchas gracias eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak

esaten zuenean la valiosa información sensible que almacenan los centros junto con el mínimo nivel de ciberseguridad y competencia digital de los usuarios del sistema

deja a los colegios en situación muy vulnerable ante los ciberataques era berean zuzenketa hau jarria dago pentsatuta bat

buenos días a todos bueno hemos asistido aquí a una defensa cerrada del

carente de inconvenientes por lo que se ve no sé si fruto del desconocimiento de lo que significa realmente o fruto de la necesidad o de la intención de politizar el software libre y convertirlo en un elemento de enfrentamiento político de apropiación de una bandera política

la solución a los problemas de nuestras escuelas ojalá ojalá fuese tan fácil como cambiar de software para solucionar los problemas de los profesores

del país o incluso para solucionar los problemas de comunicaciones o de seguridad del mundo

es un movimiento que creo que nace con objetivos nobles que efectivamente se caracteriza por la necesidad o por la libertad del usuario para modificar copiar y distribuir el software sin que nadie pueda emprender reclamaciones o acciones legales contra sin ningún tipo de licencia

es una opción que creo que merece ser analizada y merece

se habrá hecho ya en ese sentido entiendo la iniciativa

como carente de inconvenientes y como una opción que hay que imponer en los centros

y que seguramente en el futuro tendrá una presencia mayor de la que tiene hoy porque obviamente el software libre como todos los software como todas las opciones tienen inconvenientes es evidente y una de ellas es que tampoco nadie se hace responsable del mismo es decir que necesita una formación

y claro lo que está pidiendo es que de todo esto se encargue el gobierno vasco con el dinero de todos los contribuyentes es una opción repito es una opción pero hay otras encima de la mesa porque las otras que hay encima de la mesa que tienen otros inconvenientes alguno de los cuales que aquí ya se ha señalado

las tienen más o menos resueltas bueno los datos nos demuestran que la mayoría aplastante de centros finalmente se decantan por sistemas basados

yo creo que será por algo será seguramente porque les ven claras ventajas pero

que hemos visto que ya en dos mil diecisiete tenía diez trabajadores y próximamente pediremos información al gobierno sobre su actividad y su coste actual es decir

pero seamos conscientes de sus inconvenientes requiere un nivel de dominio tecnológico que la mayor parte de los centros y la mayor parte de los profesores y la mayor parte de los alumnos

no tienen tienen unos problemas de mantenimiento y adaptación que hoy nos complicarían mucho la vida y es lógico que se apueste por soluciones más cómodas y yo diría que también más sensatas

transacción en la que se exige al gobierno que materialice la pnl en el plazo de tres meses

muy práctica qué es exactamente lo que se pide que se materialice porque los puntos anteriores no hablan de nada concreto sino de que el gobierno fomente garantice el uso garantice los recursos garantice la formación no no es posible

y disculpe señores del gobierno que en esta ocasión salga en su defensa pero es que necesito entender

esta iniciativa de bildu como ya se ha dicho aquí no es la primera sobre este tema de hecho hay una larga historia al respecto

no se haya explicitado el concepto de como se había hecho anteriormente de soberanía tecnológica sin embargo

nos lo ha repetido dos veces tengo que confesar que el concepto me resulta un tanto ridículo pero si el objetivo de esta iniciativa es luchar contra molinos de viento como hizo el quijote y meter a los alumnos en medio

no cuenten con nosotros no hemos presentado una enmienda a

no tiene sentido sobre todo el enfoque con el que se ha presentado no es un enfoque razonable es un enfoque un tanto impositivo es decir todos a utilizar software libre queramos o no

este enfoque esta forma de funcionar no nos gusta mucho no sé señora gonzález no sé señora martínez ustedes no utilizan google ustedes no utilizan microsoft ustedes no utilizan apple

no sé respecto a la enmienda del pnv y del psoe tengo que decirles que estamos cien por ciento de acuerdo en su primer punto de avanzar en la alfabetización digital de los centros educativos

no tiene nada que ver con el punto que estamos tratando hoy el segundo punto

por el que se regula el modelo de gestión de las tecnologías de la información pero ninguna de las diecinueve páginas de ese decreto se habla ni una palabra de software por lo que tampoco entendemos que tenga nada que ver con esta iniciativa

cuyo contenido está bien pero que tampoco nos aporta nada a este debate y sí que anunciamos que votaremos en contra de la transacción de podemos más bildu porque entendemos que no podemos

la iniciativa privada que es mundialmente reconocida y galardonada por la iniciativa pública que sobre el papel puede tener sus ventajas

en vez de gastar esfuerzos e intentar crear un google vasco desde dentro de administración o un windows vasco igual deberíamos

y utilizar aquellas funciones que a nivel mundial resultan más exitosas busquemos las sinergias busquemos llegar al equilibrio en el que todos nos sintamos beneficiados

a los alumnos al precio más ajustado y las grandes empresas nos guste o no nos llevan mucha ventaja en esto y sospecho que nos la van a llevar mucho tiempo

en dos mil veinte microsoft y google están dando soporte a millónes de niños en todo el mundo

intentemos buscar sinergias colaboraciones mejorar la respuesta a los alumnos repito estas soluciones chromebook software libre no son excluyentes

unos y otros entiendo que esto irá avanzando poco a poco de forma colaborativa

lo van a acabar pagando quienes menos culpa de eso tienen que son los hijos en fin ustedes dan dos argumentos que son la dependencia y la falta de privacidad claro pero es que

la dependencia en un país en un mundo interconectado cada vez es mayor de todos con todos con todos los países y en todos los aspectos y que me haya dicho más de una vez en esta tribuna

es decir la interdependencia nos está llevando a una mayor homogeneización en ese aspecto y bueno esa dependencia si nos parece mal entonces seamos muy coherentes con ella y llevémosla hasta el extremo repito no utilicemos aquí

solución avanzada en el mundo y sigamos intentando inventar las ruedas sistemáticamente

que las otras soluciones que tienen en este tema un largo camino andado en fin yo creo que estamos contraponiendo soluciones que no son

que bueno ha comentado que existió que se veía un déficit en la administración de software libre y en educación concretamente

estamos de acuerdo por supuesto que hay un déficit y es la propia administración la que tiene que facilitar ese espacio para que eso se desarrolle en cuanto

esto va de un compromiso firme por parte del departamento por confiar también en el profesorado en las familias en el desarrollo de otros sistemas y no solo

los datos de nuestras hijas e hijos el que comercializa con ellos y que luego está muy ligado al

maravilloso y enorme de digitalización con el que hemos visto cómo hemos empezado el curso este año que muchos ordenadores no habían llegado otros muchos están desfasados y yo lo conozco de primera mano

que el chromebook que compré cuando empezó la eso ya no le vale entonces de eso también va esta propuesta y de eso también va

ofrecer otra vía alternativa a los centros y al profesorado y a las familias y sobre todo a los chavales y chavalas en segundo lugar sobre ejie

yo creo que se proponen igual no está escrito así pero desde ejie se tienen que desarrollar otras capacidades para desarrollar

alternativas al software privativo y se tienen que desarrollar capacidades también en el personal para que puedan dar ese soporte

me encanta porque es que nos da un montón de ideas para rebatir y para entrar en debate

la solución a nada imagínese que no va a ser ni la solución para bajar las ratios de las aulas por ejemplo

otras posibilidades y puede darlas y que no es imponer

posibilitar alternativas y eso es lo que creo que estamos pidiendo hoy y respecto al concepto de soberanía tecnológica

hay una frase anónima que dice que cuando el viento de cambio sopla

y otras construyen molinos de viento pues bueno

como concepto y bueno y que eso que otra frase es que no puede impedirse el viento pero hay que saber construir molinos eskerrik asko

básicamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho pero le quisiera hacer alguna matización sobre todo

he dicho que en el primer punto se hablaba de avanzar y tal y se hablaba siendo conscientes de lo que

en la materia había mencionado en una comparecencia allá por abril de este año

es evidente que hay que avanzar en esa implementación de conocimientos de todos los agentes tanto profesores como alumnado como

trabajadores de centros etcétera etcétera porque estamos como he dicho antes ante

pero ante una situación que requiere de mucha prudencia y de seguridad y de mucho cuidado y en el segundo punto decía usted

en el segundo punto materias como la seguridad como la administración de datos etcétera son cosas muy importantes y en las que el ámbito del software libre está bastante afectado

señora gonzález jo mire algunas veces cuando le escucho hablar

ustedes serían bastante binarios sabe porque siempre hace películas de buenos y malos cuidado cuidado que viene silicon valley cuidado cuidado que tal los buenos los malos siempre el capital

yo creo que tenemos que jugar de una manera inteligente esa manera inteligente requiere que seamos capaces de no cerrarnos

y ha mencionado usted en su respuesta un ejemplo que es el de los molinos de viento

y cuando son los del pnv los que tratan de poner molinos de viento en alguna tontorra siempre hay alguno de podemos que se opone y de bildu y esto es un ejemplo bastante generalizable a todas las materias fallos ha referido usted una serie de fallos que ha habido a principios de curso

que si hubiese sido con software libre esos fallos no hubieran existido está usted como para poder

con su permiso simplemente para agradecerle a la señora gonzález que haya confirmado que efectivamente el concepto de soberanía tecnológica es un molino de viento

veía gigantes me pregunto quién es don quijote y

en ese concepto de que es necesario avanzar y avanzar sobre todo en la formación tecnológica y yo diría que especialmente de los profesores

es decir pensamos que es necesario que hagamos una apuesta decidida por la formación de los profesores y por la formación tecnológica especialmente

la calidad de la docencia y para que puedan adaptar sus materias a las nuevas tecnologías

una proposición no de ley para su votación o para

con el grupo eh bildu después de un intento de negociación con los grupos que sostienen al gobierno pero más allá de su votación también para tener en este parlamento una reflexión y un debate

es importante y pensamos que tiene que jugar en los próximos

un papel importante debería jugar un papel importante en las políticas de salud en las políticas públicas de sanidad de nuestra comunidad autónoma la salud bucodental es una parte

hasta ahí estamos seguramente todas y todos de acuerdo afecta directamente a la calidad de vida de las personas tanto por su relación con funciones fisiológicas de gran importancia como también por su impacto psicosocial una buena atención a la salud bucodental

son esenciales para gozar de una salud óptima y para mantener

evitando diversas enfermedades en no pocos casos graves sin embargo la atención universal a la salud bucodental es una de las

de nuestra sanidad para entendernos de manera muy sencilla todas y todos los que estamos aquí y toda la ciudadanía

de ir al médico de cabecera tenemos derecho a ir a determinados especialistas

pero no todas y todos tenemos garantizado el derecho a acudir al dentista para tener una correcta salud bucodental una carencia por lo tanto que hay que abordar pensamos que hay que conseguir que todos tengamos en la práctica de manera real ese acceso a la salud bucodental

un objetivo hacia el que dirigir las políticas públicas de salud dando los pasos que haya que dar en el camino desde luego y atendiendo a los tiempos que sean necesarios para avanzar correctamente y sin prisas pero hacia ese objetivo una salud bucodental pública y gratuita apostamos por ir ampliando el derecho a la salud bucodental a todas las personas a todas las edades y en lo más inmediato y de manera concreta también en la iniciativa de hoy proponemos empezar por un colectivo que pensamos

derecho a la salud bucodental por las consecuencias evidentes y contrastadas que la falta de esta atención tiene en su calidad de vida y en el desarrollo de enfermedades potencialmente mortales como pueden ser infartos de miocardio

la pérdida dentaria genera problemas que favorecen la desnutrición de las personas mayores influye además de manera decisiva y especialmente entre las mujeres en el aislamiento social que es causa directa de la depresión

que afecta nada menos que al veintidós por ciento de la población más veterana de euskadi y de manera especial como decía a las mujeres los geriatras y odontólogos más reputados de nuestra comunidad autónoma coinciden en que existen razones objetivas para que el esfuerzo institucional se centre en el cuidado de la salud bucodental de las personas mayores

dicen ellas y ellos actúa como un desencadenante de complicaciones sanitarias que favorecen la aparición de enfermedades que ponen en peligro la vida

resulta mucho más cara de atender para los servicios sanitarios no estaríamos hablando por lo tanto de un gasto sino de una inversión en la salud de las personas de nuestro país un veintidós por ciento de la población vasca lo saben ustedes es mayor de sesenta y cinco años una cifra que va a seguir creciendo en los próximos años el gobierno vasco

estima que solo tiene sentido invertir en la salud dental de los niños entre siete y quince años así se desprende de diferentes intervenciones de la anterior consejera de salud la señora murga y así se desprende en nuestra opinión de las políticas puestas en práctica también en esta nueva legislatura por el actual

que sea universal dando los pasos que se tengan que dar que las prestaciones de salud bucodental no estén íntegramente incluidas en la cartera de prestaciones públicas en euskadi como en otros territorios ha supuesto además una afectación en la salud de las personas con un claro sesgo de clase social

y en especial para aquellas con privaciones socioeconómicas importantes y los programas públicos que alcanzan un rango de edad muy limitado entre siete y quince años con el padi a pesar de sus buenos resultados en términos epidemiológicos en la evolución de las tres últimas décadas

ni cumplen objetivos de alcanzar porcentajes de población elevada ni están corrigiendo la falta de acceso a la salud bucodental de las clases sociales más pobres de nuestro país por eso cuando planteamos también en esta iniciativa la evaluación de la eficacia del programa padi

no recogen determinados elementos fundamentales para detectar y corregir las diferencias en el acceso al propio programa de las niñas y niños de diferentes perfiles socioeconómicos ya sabemos todos que se evalúa cada año el padi conocemos

en la salud bucodental de la infancia en las tres últimas décadas incluido también hay que decirlo cierto estancamiento en la última

pero sabemos también que el porcentaje de niñas y niños que acuden al programa está lejos de los objetivos aceptables y de los objetivos que se marca el propio gobierno

más ambiciosos sabemos que los índices de caries empeoran significativamente en los niveles sociales más bajos en todos los grupos de edad los escolares de los niveles sociales más favorecidos presentan la mitad de caries que los de niveles más deprimidos pero sabemos también y esto no porque lo digan las evaluaciones del padi que hace el gobierno porque no dice nada de esto que los porcentajes de asistencia al programa son mucho más bajos

y en especial entre determinados colectivos vulnerables por lo tanto pensamos que el sistema que tenemos más allá de esos buenos resultados en términos epidemiológicos para determinadas franjas de edad y sin valorar las diferencias socioeconómicas de quienes niñas y niños acuden a él pensamos que de manera global el sistema que tenemos parece que lejos de caminar hacia ese objetivo de salud bucodental universal está propiciando en cambio que no se invierta en la sanidad pública en este campo

de siete a quince años sin embargo pensamos que esta política

y este es un debate que pensamos que también se tiene que abrir en este parlamento se ha venido beneficiando el sector privado de

está lastrando a la pública y eso desde luego es una preocupación de primer orden para elkarrekin podemos izquierda unida si no se invierte en sanidad pública

si no se invierte en desarrollar la capacidad del sistema público de salud para atender la salud bucodental cómo vamos a conseguir nunca una cobertura

el objetivo para mi grupo desde la puesta en marcha del padi el número neto de profesionales de la

en este momento hay más de novecientos dentistas habilitados por el departamento de salud en más de ochocientos clínicas privadas

de dentistas en osakidetza en dos mil veinte

haber acudido al padi sesenta fueron atendidos por dentistas concertados treinta y siete que no es un número bajo no acudieron a la revisión y solo tres acudieron a dentistas de osakidetza más del noventa y cinco por ciento de la atención del padi se realiza por dentistas privados concertados

se destinan de los presupuestos públicos casi cinco millónes de euros por el contrario el número de niños

no ha dejado de reducirse desde los años noventa y si no se corrige esto

nosotros proponemos también abrir ese debate para revertir ese modelo concertado que es por el que también en esta materia está

no compartimos y por último buscamos también fortalecer las actividades de promoción prevención y asistencia de salud bucodental en todos los centros de salud y ambulatorios

disminuyendo las desigualdades sociales este es un objetivo importante y mejorando la salud bucodental de la ciudadanía y particularmente

de los mayores de sesenta y cinco años y de las personas más vulnerables por eso pensamos que es necesario no solo hacer un balance de los recursos

sino de cómo se utilizan pensamos que es hora de apostar por una financiación y prestación pública de los servicios de salud bucodental

pero también pensamos que es una necesidad para poder avanzar en ese objetivo de garantizar en el futuro una salud bucodental universal

y para todos nosotros con la iniciativa de hoy pensamos que no se ha alcanzado un acuerdo porque creemos que el gobierno vasco echa balones fuera en concreto con ir dando pasos hacia la salud bucodental para mayores de sesenta y cinco años nosotros estamos de acuerdo con que se impulse como proponen pnv y partido socialista

y con el ministerio la inclusión de estos servicios de salud bucodental en la cartera común

del conjunto del estado pero aquí en euskadi tenemos la capacidad perfectamente la capacidad normativa para ir dando pasos también e implementar

ese tipo de derechos si se consigue en el conjunto del estado donde nosotros desde luego también empujaremos y en estos momentos desde nuestra presencia en el gobierno en madrid

para euskadi y será una excelente noticia para el conjunto de comunidades autónomas pero nosotros no entendemos por qué un gobierno capitaneado por el partido nacionalista vasco que muchas veces es muy celoso de las competencias y reclama que hay cosas que madrid no le deja hacer que reclama que no se completa la transferencia de competencias

cuestiones políticas sobre las que pueda actuar sobre derechos de las personas estamos hablando de salud pues parece que prefiere echar balones fuera y esperar

estos elementos nosotros pensamos que si hubiera voluntad política por parte del gobierno hay mimbres suficientes

abrir este debate aquí en euskadi y ver si hay voluntad política de ir dando pasos para ampliar esa salud bucodental más allá del programa padi para niños de siete

la capacidad para implementar programas que vayan más allá de lo que está incluido en la cartera común de servicios nuestra pregunta es

no se hace nosotros esta es nuestra propuesta reclamamos al gobierno vasco avanzar en estos derechos aquí en euskadi porque pensamos que podemos hacerlo perfectamente y sobre todo porque como decía al principio pensamos que en los próximos años el derecho a la salud bucodental desde lo público

por una parte decía que este tema se ha debatido en numerosas ocasiones en el parlamento vasco no es la primera vez a raíz también de iniciativas legislativas que hemos impulsado por parte anteriormente del grupo popular se han alcanzado acuerdos en relación a mejorar

de las personas mayores de sesenta y cinco años como el propio padi programa de atención bucodental infantil que da cobertura a las niñas de siete y quince

y por lo tanto creo que es un tema que es de interés para la ciudadanía vasca y para colectivos concretos voy a pasar

el acuerdo al que hemos llegado y los puntos concretos a los que hace referencia hablamos de continuar evaluando anualmente el programa

con el objetivo de mejorarlo sabemos que es un programa que funciona bien se hace un informe anual sobre este programa pero también

introducido un segundo punto en esta enmienda de transacción que lo recogíamos en nuestra enmienda de totalidad que es hacer una mención expresa y hacer hincapié mejor dicho en aquellos colectivos que específicamente estando dentro del programa dentro de la cobertura del programa no realizan un uso sistemático

que podrían hacer utilización de este programa y no lo hacen y en ese sentido creemos que se pueden poner en marcha campañas

en relación a estos niños para que aumente la cobertura del programa del padi por otra parte

mayores de sesenta y cinco años o los colectivos más vulnerables

pero sí que entendemos que al final estamos dentro de un sistema nacional de salud

a las competencias que teníamos en planificación sanitaria y que hemos entendido que en algunas ocasiones el

un uso adecuado dejación de las mismas sin perjuicio de que hay aspectos que venían dados por los acuerdos en la comisión nacional de salud y en el consejo interterritorial pero en este caso sí que entendemos y dado que ya hay

que hay informes específicos sobre este tema que se impulse en el seno del ministerio de sanidad entre el propio

mejor dicho entre el ministerio de sanidad y las comunidades autónomas la posibilidad de ampliar la atención bucodental dentro de la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud tanto para las personas mayores de sesenta y cinco años como

a los menores hasta los quince años y especialmente los más vulnerables nosotros creemos que es el camino nosotros también tenemos no es el caso

y en este sentido en la medida de lo posible sí nos gustaría que

en la atención bucodental que se presta al conjunto de los ciudadanos

pueda ser abordada como ya se está haciendo de hecho en un órgano común y en donde yo creo que es positivo que se vaya de la mano con todas las comunidades autónomas sin perjuicio digo de las competencias específicas

otros programas o la cobertura de ciertos

y por otra parte nos ha parecido importante y también lo recogían los grupos que apoyan al gobierno en su enmienda de totalidad una referencia específica a fomentar estilos de vida saludables en aras

enfermedades bucodentales y también poniendo el énfasis que para nosotros es importante una especial referencia a las personas mayores y

colectivos más vulnerables yo puedo entender los argumentos del grupo proponente pero creo que sinceramente

porque echo en falta la ambición de este gobierno en política social en sanidad

el mismo ímpetu que demostráis con los proyectos basados en el cemento ze

para mejorar la vida de la ciudadanía y por nuestra parte exigimos al gobierno ambición ambición y volver al pelotón de cabeza trabajar por la excelencia y por la mejora continua y para ello entendemos que el programa actual

las necesidades de la ciudadanía esan bezala gaur hemen

gracias señora presidenta igual ahí se ven dos caminos

marcado un objetivo desde hace tiempo y seguimos en marcha para conseguirlo y para dar resultados y seleccionar los problemas de la ciudadanía con el rumbo perfectamente claro establecido sin parar ni un solo momento en conseguir lo que aquí en esta misma cámara nos hemos comprometido y el rumbo de otros

cambiar cada legislatura de postura y plantear cuestiones novedosas incluso con los acuerdos que se han suscrito en esta cámara con ellos mismos yo creo que hemos hecho un ejercicio

un acuerdo en este ámbito porque existen importantes coincidencias en el ámbito de la salud bucodental el problema es que hay veces

hay quienes intentan buscar la diferencia cuando sería mucho mejor para la ciudadanía vasca que nos ha puesto aquí que busquemos el punto de acuerdo y creo que la coincidencia fundamental en este ámbito es precisamente la de haber avanzado en el tiempo y haber ido incorporando

de ir incorporando progresivamente la salud bucodental en nuestro sistema público de salud y eso no ha sido así desde el principio solo hay que ver los debates en esta cámara y en cualquier otra cámara existe un principio común de acuerdo que yo creo que es lo que tendríamos que de relevancia pero es que además esa coincidencia no es nueva lo hemos visto en legislaturas anteriores no es verdad que es la primera vez que hablamos en esta legislatura de este tema pero en la legislatura anterior en las legislaturas anteriores

los consensos volveré a esto posteriormente se ha hablado del padi

fuimos pioneros con el padi y eso yo creo que es algo que tenemos que admitir todos que en ese programa de asistencia dental a

y creo que es un ejemplo de éxito y cuando algo se hace bien también hay que decirlo que el setenta y seis por ciento en el año dos mil veinte de los niños menores de doce años estuvieran libres de caries en euskadi

por lo menos que ser definido como positivo como positivo y que sea un éxito

porque entonces moriríamos de éxito claro que tenemos cosas

y en eso estamos en eso estamos los socialistas y en eso es en lo que estamos

de los mayores de sesenta y cinco años y de las personas vulnerables y en esa pasada legislatura hubo acuerdos

lo que veremos es que se están cumpliendo

a mí la primera cosa que me llama la atención es que cuando en un acuerdo que se firma se fija un rumbo se venga ahora a reclamar

a lo que se venía acordando uno de los puntos más importantes de esos acuerdos transversales en los que

no estuvo en la pasada legislatura era el de instar al

llevara una reflexión sobre la cartera de servicios comunes del sistema en el ámbito de salud bucodental

y es que lo estamos haciendo si ustedes cogen punto a punto lo que se aprobó en la pasada legislatura se está haciendo y eso es lo que estamos haciendo por cierto

entre el partido socialista y unidas podemos que se recoge elaborar un plan de salud bucodental que establezca las prestaciones a cargo del sistema

se incluye una acción específica en el marco estratégico de atención primaria lo estamos haciendo en febrero de dos mil veinte

que se está haciendo un análisis con las comunidades autónomas para determinar los aspectos prioritarios

del impacto presupuestario y que se va a proceder a definir una nueva cartera de servicios bucodentales

que requeriremos consenso entre las comunidades autónomas y seguir el procedimiento establecido y julio de dos mil veintiuno publicación de la consulta pública del proyecto de orden ministerial de modificación

el que recoge precisamente la cartera de servicios comunes que creo

bucodental por lo tanto los socialistas creemos que la salud bucodental es verdad que es una materia pendiente del ámbito de la salud pública en nuestro país y además tiene muchas derivadas y tiene muchas consecuencias para la salud en general

además marca desigualdades evidentes y eso es verdad

y quien no lo puede pagar y eso incluso cuando encima no tienes la mala suerte de que la empresa en la que confías no te cierre dejándote en la estacada como hemos visto con dentix etcétera

y porque es una desigualdad nosotros los socialistas estamos absolutamente empeñados en erradicarla y en acabar con ella simple y llanamente y hemos acordado introducir progresivamente la atención bucodental en el sistema salud pública y estamos buscando el consenso con las comunidades autónomas pero es una decisión política adoptada y que vamos a cumplir no les quepa

sin engañar a nadie sabiendo que esto va a ser de forma progresiva

consensuada porque pedirlo todo y ahora es muy sencillo el papel lo sostiene todo pero la realidad es que esto va a ser una incorporación progresiva todos lo sabemos nosotros creemos que

más amplio es porque no se ha querido llegar a ese acuerdo más amplio porque en el fondo creo que todos los que estamos sentados aquí sabemos que lo que va a pasar

eguerdi on guztioi hoy debatimos una proposición no de ley relativa a los servicios de salud bucodental en la que no ha sido posible un acuerdo con el grupo proponente ni con eh bildu a pesar del importante y sincero esfuerzo que hemos hecho

la plena disposición del gobierno y nosotros desde luego hemos hecho unas importantes cesiones de lo que era nuestra posición de partida de nuestra posición inicial hemos ofrecido una revisión dental la posibilidad de valorar o

a los cuatro años de seguir mejorando impulsando esa cartera de servicios que entendemos que es el paso previo

a facilitar un desarrollo normativo pero bueno como el grupo proponente y eh bildu se han querido quedar en sus posiciones iniciales maximalistas y no se han movido nada respecto a lo suyo inicial

no es posible no se pueden llegar a acuerdos nosotros somos conscientes que hay margen de mejora y en eso coincidimos todos pero aquí es necesario un equilibrio

de unas cuestiones que repercuten que llevan añadidos o aparejados unos importantes compromisos económicos y bueno lo que se ha visto hoy aquí es que se quería que se han querido mantener estos dos grupos han querido mantener el discurso de las esencias y bueno si ese era el objetivo el discurso un discurso

no se puede decir que han venido ustedes hoy aquí a avanzar a querer avanzar a conseguir acuerdos y seguir avanzando en este servicio público

nosotros haciendo un ejercicio muy realista y responsable entre lo posible y lo deseable hemos conseguido llegar a un acuerdo con el partido popular ciudadanos agradeciendo la disposición de la señora garrido y nuestra premisa siempre es la misma justificación técnica una base técnica científica y sostenibilidad económica desde la financiación pública

en concreto tres proposiciones no de ley que hoy más o menos se hacen en una en la que hubo importantes acuerdos que hoy seguimos poniendo en valor porque como ha dicho el señor rico

un hito y que hoy se podía haber seguido avanzando en esa línea pero bueno pues no se ha querido los

pero bueno hoy parece que ha querido cambiar de rumbo o mantenerse en un discurso más esencial no sé como

me remito a por no repetir absolutamente todo me remito a mis intervenciones en aquella ocasión a las actas a mis

intervenciones relativas a la salud bucodental

por no repetir en la medida de lo posible todo aunque evidentemente hoy actualizamos

lo nuevo o lo que se añade respecto a aquella ocasión

también creo que esos debates y unos debates tan sectoriales probablemente el foro y con todo el respeto el foro más adecuado pueda ser la comisión pero bueno un comentario

eso que ofrecíamos y habiéndonos quedado en nuestra enmienda con el acuerdo con el partido popular bueno

continuar evaluando anualmente la eficacia del padi contando para ello con la participación de agentes profesionales y representativos del sector

padi programa de atención dental infantil pues que fue un programa pionero en euskadi que se inició en los años noventa que atiende a niños de entre siete y quince años pero

para toda la vida y además que afecta a diferentes generaciones hoy en este momento la primera generación que disfrutó o que pudo disfrutar del padi tiene treinta y ocho años y se considera con base técnica

esa generación es más sana que las anteriores y aquí también destacar que el compromiso del gobierno vasco

pues que ha sido permanente y fundamental también ahora si cabe destacarlo en épocas de crisis como las que hemos vivido como sabemos el padi se evalúa anualmente en un informe anual

hace de forma participada con los agentes más representativos del sector

en las evaluaciones se evalúa su eficacia

que es muy completo pero bueno siempre hay margen de mejora y desde luego

en cualquier caso el último informe el del dos mil veinte los datos de ese ejercicio y a pesar de haber sido un

que la asistencia a las consultas y demás han quedado afectadas los datos han sido muy buenos ha habido

está demostrada el noventa y cuatro por ciento de la población de quince años de edad en euskadi ha pasado ha utilizado el programa es verdad que la utilización anual es menor el porcentaje de utilización anual es menor que ronda el sesenta y dos bueno sesenta y dos coma setenta y uno por ciento exactamente pero aquí lo importante es ver puede que en un año concreto no se haya utilizado

aquí lo importante es destacar o combinar esos datos ese sesenta y dos con el noventa y cuatro por ciento que es

utilizar ese programa y aquí estamos a la cabeza de las comunidades autónomas otra cosa es que se siga insistiendo y así lo hemos recogido en nuestro acuerdo que se siga insistiendo en las campañas para que este programa

y por otro lado otro indicador muy importante y esto es muy en resumen porque evidentemente el informe anual es muy

extractando algunos de los datos más significativos pues en cuanto a la población libre de caries

pues ya sabemos que es en niños de catorce niños niñas de catorce años

los resultados del programa o la repercusión en la salud de la población en general pues es evidente y por otro lado nosotros en nuestra enmienda

pedimos que se impulse en el marco del consejo interterritorial la ampliación de esa cartera de servicios aquí ya se ha dado un paso se ha ampliado o sea se ha llegado a un documento de consenso en el que se incluyen algunas la posibilidad de aplicar unas nuevas prestaciones

personas en procesos oncológicos personas con alguna discapacidad y evidentemente no se está aquí no se está renunciando a ninguna competencia

que el paso lógico es que primero esté incluido en la cartera

y después nosotros lo vayamos desarrollando evidentemente no va a haber una renuncia

un contenido político de querer unificar o esa renuncia a las competencias

insistimos en la mejora en seguir promoviendo acciones comunitarias en la promoción y prevención de la educación porque entendemos que la tendencia debe ser la prevención y no la reparación y así en este aspecto bueno pues ya se realizan importantes acciones algunas más con mayor de mayor cuantía otras más sencillas pero bueno

una revisión a los cuatro años ligada a la revisión pediátrica que corresponde que bueno aunque no prosperara este punto pues evidentemente el departamento de salud seguirá

y entonces lo que resulta lo que desde luego resulta inasumible es ir a un cien por ciento de lo que ustedes piden es ir a un cien por ciento de cobertura en las franjas que ustedes piden de la noche a la mañana en este momento resulta inasumible otra cuestión es que se siga avanzando por el camino que hemos dicho de la cartera de servicios comunes que evidentemente euskadi está en ello

todo cuando tiene unos compromisos económicos muy importantes y en cuanto al sistema público privado pues a ver aquí el sistema es

con la colaboración privada el sistema los servicios no dejan de ser públicos y

de la privatización pues que no procede y sin más los avances son evidentes y el departamento

gracias señora presidenta buenos días de nuevo a todos hoy vamos a votar

y pp ciudadanos por ser la que más se ajusta a aquello que defendemos desde vox en concreto avanzar hacia una atención sanitaria igual en todo el territorio nacional

homogénea en toda españa y a que el nivel de esta atención sanitaria también bucodental sea de la máxima calidad posible en cualquier punto de la geografía española

y para garantizar que podrá beneficiarse de esto toda la ciudadanía española también estamos de acuerdo en el estudio de las posibilidades reales de incorporar la atención bucodental a menores hasta quince años mayores de sesenta y cinco y por supuesto colectivos vulnerables

que se incidiría que además incidiría en una mejor salud dental de la población pero teniendo en cuenta eso sí el tiempo de profunda crisis que sufrimos habría que tener en cuenta por tanto los impactos de la ampliación del sector público

implicados y cómo no apostamos por supuesto por la evaluación constante permanente de cualquier servicio

por lo cual sumamos el voto de vox a esta enmienda transaccional porque la consideramos una buena propuesta para la ciudadanía vasca dicho esto en cuanto al grupo

es bildu creemos que hay que estar vigilantes por su insistencia

fomentando y amplificando una visión sesgada de lo que representa en un país como españa en el que el estado de bienestar se sustenta además en buena parte en la actividad y compromiso de empresarios y autónomos es decir en lo privado

que la iniciativa privada también necesita apoyos y reconocimiento qué podemos decir de la ley vasca de salud bucodental nos sorprende más aun viniendo de un partido que conforma el gobierno de españa como podemos que de cara a la galería

en esta cámara se sitúa siempre al lado independentista insistiendo en la diferenciación entre españoles y no igualándonos a todos en cuanto a salud siempre apoyaremos iniciativas que vayan en este sentido y en esta ocasión consideramos positiva esta enmienda transaccional en la que se incide en la cobertura nacional

común señor rico y el acuerdo común es que todos estamos de acuerdo en que la salud bucodental es muy importante pero por supuesto no existe un acuerdo común de consenso con todos los grupos como usted ha dicho eso no es cierto en esto tenemos holguras y además deficiencias notorias en esta cámara

del otro aquí no juega la ideología ni el discurso partidista estamos de acuerdo aquí juega ahora mismo la integridad bucodental de toda la sociedad vasca y creo que en ese punto

respecto a esta cuestión de la pasada legislatura a esta y además he tenido la ocasión de charlar estos días con nuestro querido

el parlamentario de nuestra coalición que llevaba estos temas en la anterior legislatura y además repasando

decía mantenemos las mismas posiciones y el mismo discurso hemos llegado a acuerdos puntuales acuerdos que nosotros ratificamos

de nuestra coalición que ha ido impulsando cuestiones concretas para la mejora de la atención a la salud bucodental en euskadi pero reiterarnos en los acuerdos cuando un grupo como el nuestro trae una iniciativa pues entenderán ustedes que para elkarrekin podemos e izquierda unida no es suficiente

los acuerdos una y otra vez pero creo que eso no tendría sentido lo que tiene sentido para traer de nuevo al parlamento y nosotros pensamos que sí el pleno es un buen sitio para discutir de una cosa o de un tema cuando se le quiere dar trascendencia e importancia y nosotros queremos darle trascendencia e importancia

intervención a la salud bucodental en la sanidad pública en los próximos años porque pensamos que es una carencia que tenemos y creo que se ha compartido también por algunos de los grupos

que apoyan al gobierno y nosotros no nos quedamos en ninguna esencia de hecho nuestra iniciativa está muy lejos de ser una iniciativa de esencias

cuestiones concretas que yo pueda entender que son ambiciosas efectivamente y que puedo entender y que así lo he dicho que hay cuestiones que no es posible aplicar de la noche a la mañana como ha explicitado la señora

nadie ha ofrecido hablar la implementación de atención

en euskadi ustedes se refieren y lo derivan a esos acuerdos a nivel estatal acuerdos que como digo

sino que mi coalición va a defender en eso estamos de acuerdo y una cartera común para el conjunto del estado nosotros siempre vamos a estar de acuerdo y siempre vamos a defender

haciendo pero en euskadi se puede avanzar también en empezar a garantizar estos derechos de manera paulatina y en este caso concreto lo proponíamos a las personas mayores de sesenta y cinco años por una cuestión muy concreta porque

los expertos nos están diciendo que este colectivo necesita hoy en día de esa atención que tal vez hace treinta años no tenía tanta necesidad

que hoy en día sí por eso nosotros pensamos señor rico que para demostrar esa hoja de ruta que usted dice compartir

de una salud bucodental pública universal y gratuita entendemos que compartimos ese objetivo

y creo que para avanzar hacia ese objetivo hay que demostrarlo con hechos yo creo y así he expuesto que las políticas que tiene en marcha este gobierno en estos momentos no avanzan en ese sentido porque mantienen lo que hay mantienen de momento el padi como está

a ver qué hacemos con el resto de comunidades autónomas y con el ministerio por eso no nos quedamos en las esencias por eso no podemos llegar a un acuerdo que a nosotros desde luego nos hubiera gustado a mí me hubiera gustado salir hoy de aquí diciendo bueno he traído una iniciativa

que apoyan al gobierno pero no había nada de eso no había nada concreto en estos momentos y pensamos que hay que demostrarlo con hechos nuestra crítica al padi

y señalamos cuáles son las carencias y que creo que las compartimos

creemos que luego no se hace lo suficiente para corregirlas por eso creemos que faltan yo he leído

y faltan elementos para saber exactamente dónde están esos colectivos vulnerables a los que luego décimos y han acordado ustedes que se van a dirigir determinadas campañas

para no poder avanzar hoy al menos en esta propuesta que nosotros traíamos creo que la ha dicho la señora larrauri recursos económicos

acabamos hablando de duros creo que es lo que está detrás nosotros somos conscientes de que esto requiere un esfuerzo económico y estamos dispuestos a hablar de esfuerzo económico pero primero habrá que ver queremos hacerlo y luego vamos

según el coste porque yo cuando salgo a la calle a mí me llama mucho la atención claro que esto tiene un coste importante pero

que se van a gastar trece millónes de euros en hacer un nuevo pinchazo

en rehabilitar la isla y colocar la famosa escultura pues yo me pregunto amaitu mesedez este tipo de cuestiones sabemos

pero son fundamentales salud bucodental besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

denbora gutxi bueno tengo la sensación de que este gobierno

y punteros ya pero éramos

que no se puede vivir de las rentas que estamos en el dos mil veintiuno que el programa padi es de mil novecientos noventa ez dakit

al señor rico que se está haciendo pues si se está haciendo yo creo que podíamos haberlo

y no hemos llegado y no es que no hayamos llegado sino que la última propuesta que

recibí en la que se incluía analizar

analizaremos la implantación en la revisión de los cuatro años

analizando observaremos veremos veremos konpromiso eza horrek guri

servicios población española cobertura nacional eta control del gasto

ver algunas de las cuestiones que se han dicho aquí porque lo único que

en la primera idea con la que yo he comenzado mi intervención y es que si hoy no se ha llegado a un acuerdo más amplio es porque hay gente que no ha querido llegar a ese acuerdo punto punto porque hay un principio de realidad que todos compartimos claro se puede venir aquí a decir claro vienen con el costo ya es que a mí me gustaría tener esa

maravillosa o la varita mágica que tienen ustedes para no preocuparme también de efectivamente las implicaciones presupuestarias que tienen las cosas ojo que esto es lo verdaderamente divertido que no les importa aquí porque luego me voy a los municipios que gobiernan

cuarenta y nueve millónes de euros hemos metido en los anteriores presupuestos para toda españa

no es todo lo amplio que usted y yo quisiéramos pero sabemos que es el primer paso que ha puesto el gobierno de españa

como yo allí y aquí porque se lo he dicho antes es que

todos y es que hay una visión global hay una visión conjunta de todos los representantes de esta cámara y de todos los representantes en todas las cámaras de que la salud bucodental es una asignatura pendiente y eso no era lo que pensaban

que yo creo que es de lo que nos tenemos que alegrar evidentemente no se puede pasar de cero a cien en un año en dos años yo no me voy a poner porque no tengo

ni bolas mágicas para ver el futuro pero todos sabemos que esto se va a conseguir de forma progresiva de forma paulatina y si en españa hay un gobierno de izquierdas durante todos estos años

nos costará un poquito más pero esto se va a introducir

la cobertura sanitaria porque es una cuestión de justicia y hemos aceptado todos que es una cuestión de justicia lo que se trata yo creo

si el rumbo lo teníamos muy bien fijado en la legislatura pasada si cuando

el punto tercero de esa enmienda transaccional hablaba claramente de dónde teníamos que actuar y era ir junto al gobierno de españa

de los pasos que se han dado es que es lo que estamos haciendo pero porque es lo serio es que cuando la legislatura pasada acordamos con elkarrekin podemos

hicimos lo lógico si volvemos a hablar en esta legislatura que posiblemente hablemos de salud bucodental a mí me gustaría que lo que ha pasado hoy

y volvamos a reconducir una situación que creo que está bien encaminada de verdad creo que está bien encaminada el padi señor iriarte lo tenemos que mejorar efectivamente pero como se ha empezado como se fue mejorando desde los años noventa

incorporando hemos ido haciendo actuaciones hemos ido informando para que cada vez sean más

que acuden a ese programa y como hay que seguir haciendo evidentemente evidentemente y si hay un elemento que yo sí quiero destacar también

el padi es un modelo de éxito y es un modelo de éxito que nosotros compartimos y del que estamos orgullosos porque hemos formado parte desde siempre pero de lo que estamos hablando ahora es de integrar la salud

en lo público es otro paso más es un paso complicado como ustedes saben pero que lo vamos a dar no estamos hablando de un esquema padi no estamos hablando de otra cosa que lleva mucha y en eso es en lo que estamos los socialistas por eso les decía que sin engañar a nadie sin decir que esto va a ser deprisa y corriendo

es en integrar la salud bucodental en la cartera de servicios desde lo público y en eso es en lo que estamos los socialistas nada más y gracias

legebiltzarburu andrea señor hernández hoy el acuerdo

de lo que se puede ofrecer como digo con una base técnica y con una sostenibilidad

se ha ofrecido se ha hecho un gran esfuerzo en ofrecer una revisión adelantar de los siete a quince años adelantar una revisión a los cuatro años evidentemente se pone ponía analizar

que lleve a una revisión de los dentro los cuatro años y además después en caso de encontrar problema

eh bildu hablaba de especialistas en general que también podía ser un privado no ahí desde luego se había dado un gran paso pero evidentemente para decir que se realice

hay que decir cómo cómo entonces ese era el protocolo es decir no puedes lanzar no se puede lanzar decir que se realice la revisión y entonces al día siguiente los pediatras dicen y yo cómo lo realizo no o sea

ese paso previo desde luego era el protocolo y ahí estaba ofrecido y desde luego

ustedes lo habían propuesto pero es que en esto ya se está trabajando y yo creo que ese era un importante paso que se podía haber mencionado de forma expresa y desde luego el departamento de salud ni el gobierno vasco no vive de las rentas aquí se está avanzando y se está mejorando cada día evidentemente quedan muchísimos pasos por dar pero ni el gobierno vasco ni el departamento de salud ni osakidetza viven de las rentas el padi evidentemente efectivamente empezó

en ese programa se han introducido muchas mejoras hay dotación económica anual que se va incrementando que se ha ido incrementando cuando se ha podido es decir que eso no está estanco eso sigue en marcha otra cosa es que se pusiera en marcha evidentemente

y dicen que es un programa exitoso pionero

bien tendrá margen de mejora pero hombre que es medieval y

el tema de la cobertura efectivamente se están dando pasos y el primer paso entendemos que es y se ha dado un paso ya muy importante se ha llegado a un documento de consenso en el seno del consejo interterritorial de salud bien el estatal pero es que es lógico llegar a unos puntos mínimos que después las comunidades autónomas podremos desarrollar y evidentemente euskadi

unas bases mínimas comunes que se pueden fijar porque usted ya sabe las consecuencias que tiene y como eso es el paso lógico

y otros muchos colectivos y ahí luego habrá un punto de decisión

no se puede decir o descartar no claro vamos a hacer hombre sí vamos a hacer pero

o un sustento habrá que tener previamente hecho un análisis económico de lo que supone la obligación que se está adquiriendo y evidentemente ahí estamos ahí están los sesenta y cinco años y ahí se va a avanzar pero lo que no se puede es lo que usted propone en su enmienda

ustedes han dicho esta es la propuesta nosotros hemos intentado avanzar y ustedes en ningún momento han dicho

de unos pasos intermedios y bueno en cuanto a lo privado y público

de la salud bucodental en la atención primaria y en eso se está pero en este momento el sistema concertado funciona tiene sus ventajas

presidenta buenos días consejero señorías bien acuerdo de transacción el parlamento vasco muestra

a los actos de violencia y enfrentamiento con la policía que se han producido en ciudades y pueblos del país vasco las últimas semanas

actitudes insolidarias e incívicas de determinadas personas que perturban la convivencia ciudadana incumpliendo además las normas sanitarias establecidas

de la pandemia el parlamento vasco muestra su apoyo y respaldo a la policía del país vasco en la labor que viene desempeñando para garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria dictaba

bien hemos alcanzado este acuerdo con los grupos que apoyan al gobierno en lo relativo al presente punto y desde luego

la del otro grupo elkarrekin podemos que ha presentado una

enmienda luego me referiré a ella hemos vivido y seguimos viviendo en el país vasco durante muchas semanas este último verano tardes noches madrugadas de actos de vandalismo

en el marco de botellones de quedadas ilegales de distintas algaradas y es necesario ahora que la sociedad reciba

la condena de lo sucedido que está causando mucha inquietud mucho temor mucho miedo a vecinos y vecinas de muchas localidades y que también se vea que se recibe que reciben el apoyo quienes fueron atacados insultados por cumplir con la obligación de mantener el orden público hemos de ser

y en el apoyo a la policía se han visto escenas de violencia ataques y también lamentablemente en muchas ocasiones hemos visto una policía

tenía serias dificultades para hacer que la ley encontrase

hemos visto esas dificultades bien cuando trataban de controlar esa hostilidad abierta y organizada situación que desde luego que se ha analizado y que

sindicales de la policía vasca porque no voy a reproducir pero no es

esas dificultades esa situación a veces un tanto desbordada pero bueno en cualquier caso lo que tenemos que hacer es apoyar y respaldar el trabajo de la policía

locales bilbao san sebastián vitoria

galdakao hernani mundaka entre otras han sido escenarios donde

las actitudes antisociales se han manifestado este verano

a través también de la información que nos han dado los medios de comunicación también hemos visto a alcaldes de

miembros del gobierno al propio lehendakari a hacer llamamientos a no llenar las calles de enfrentamiento de actitudes violentas pero en muchos casos esa radicalidad

ha respondido con todo lo contrario con desoír esas propuestas y

a la diversión sí pero a la convivencia y desde luego eso es lo que ha ocurrido nula respuesta a muchos de esos llamamientos que han hecho las autoridades en este caso muchos alcaldes lo hemos visto todos en nuestras ciudades y de

incidentes orquestados no hay improvisación en la mayoría de esos encuentros todo estaba organizado todo estaba

empleado la denominación no fiestas hombre como rebajando como en ese marco de insatisfacción de las no fiestas

ya sabemos que lo que ha ocurrido estaba perfectamente organizado quedadas ilegales redes sociales

es lo que ha ocurrido y lo que nosotros debemos analizar y condenar

por ello también además de esta proposición no de ley

hemos enviado al gobierno una pregunta y una solicitud de información para

conocer los hechos con exhaustividad también valorar las responsabilidades de lo ocurrido

de lo sucedido estos días y por eso la solicitud de información que presentamos al gobierno

en nuestras ciudades en estos meses desde luego donde ha habido esos hechos las numerosas personas detenidas en relación con estos incidentes como solicitud de información y también como pregunta

esa valoración después de lo que ha ido ocurriendo del departamento

y donde se puedan identificar qué responsabilidades qué mecanismos

y ese enfrentamiento buscando precisamente el enfrentamiento con la policía

en todo caso como decía han sido muchas las localidades vascas en las que se han producido

esos actos de violencia y esos enfrentamientos con policía municipal y ertzaintza esas expresiones y actitudes incívicas

han sido vuelvo a repetir en el marco de esas mal denominadas no fiestas en esas quedadas en esos botellones ilegales en esas concentraciones no autorizadas donde grupos de personas radicales han promovido graves incidentes existe una importante relación de situaciones violentas que todos conocemos que se han producido en nuestras calles y plazas

ataques a intereses públicos y privados vulneración de la normativa de salud pública diversos delitos que se han producido de una manera sistemática quema de contenedores y mobiliario

ataques a comercios que todos lo hemos visto ataques a intereses privados a comercios agentes contusionados o sea en ese sentido ahí está lo que ha ocurrido y sobre lo que tenemos que analizar y pronunciarnos desde este parlamento también las policías autónoma

detenciones han tenido que realizar muchas identificaciones de muchas personas radicales participantes en las algaradas en los botellones y en esas quedadas

está claro que y por eso nuestra solidaridad muchos agentes han sido heridos como decía han tenido que requerir asistencia sanitaria contusionados y en ese sentido ahí está y lo hemos visto y somos testigos y desde luego

y la solidaridad por parte del gobierno y tiene que venir por parte de todos en relación con esos

a muchos agentes a urgencias o al hospital o a los servicios sanitarios nosotros estamos convencidos

se identifica en relación con estas cuestiones el enfrentamiento los incidentes contra

contra la policía que representa la autoridad eso no es un caso aislado

eso es una marca la marca de la radicalidad que todos conocemos la marca del odio la marca del odio en este caso al representante de la autoridad a la policía a la policía autónoma a la policía municipal esa marca está ahí nosotros estamos convencidos de ello yo quiero decir para concluir después del acuerdo alcanzado que es necesario un planteamiento de estas características

actitudes contra la convivencia actitudes antisociales queremos fomentar las actitudes sociales la contundencia en el respeto a las reglas del juego yo

este turno por parte de elkarrekin podemos yo le agradezco la enmienda de totalidad agradezco al grupo de elkarrekin podemos

básicamente básicamente con nuestra iniciativa y con la iniciativa y con el acuerdo condena de los actos violentos y ataques

locales eso es lo básico y fundamental es muy interesante

usted hace yo creo que introduce una serie de cuestiones al margen de esas específicamente

sobre las que hay que hablar y forman parte de un debate interesante pero que yo creo que es un debate diferenciado en este momento estamos hablando de lo que ha ocurrido identificando hechos y tratando de apoyar o de ser solidarios con

podemos hablar del modelo policial porque en definitiva usted también habla de la proporcionalidad la necesidad

yo creo que eso es otro debate hoy o podemos hablar del ocio

y de los modelos de ocio podemos hablar también de la juventud

de que son temas muy importantes pero yo entiendo que hoy el mensaje tiene que ser claro tiene que ser nítido en el sentido

la mayoría del parlamento ha entendido así nosotros queremos ser claros en el rechazo

que afectan a la convivencia y queremos ser contundentes en esa condena y también muy claros clarísimos en el apoyo en la solidaridad en el afecto a la ertzaintza y a la policía local en sus importantes en sus

ellos son protagonistas claves de la convivencia democrática y desde luego a ellos hoy también nuestro homenaje muchas gracias eskerrik asko

iniciativa y sobre todo este asunto elkarrekin podemos izquierda unida rechaza y condena las actitudes irresponsables e insolidarias ante la covid diecinueve

policía que no pueden tener en este caso nuestro apoyo además sí es su trabajo lo realizan conforme a los principios de proporcionalidad e idoneidad y como siempre además en este momento en el que la situación de pandemia mejora seguimos apelando también a la responsabilidad y al cuidado colectivo

behar dugu durante toda esta pandemia hemos llamado al cuidado colectivo a defender la protección colectiva a la pedagogía a cuidarnos entre todos y entre todas no solo a las personas jóvenes que también hay una minoría que incumple sino a todas las personas

que tengan en todo caso nuestra enmienda que es más completa que pensamos que el acuerdo al que se ha llegado viene por una reflexión que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo y después de ver imágenes también con jóvenes

tirar a dar en una actuación policial por tanto nosotros seguimos pensando

proporcionalidad idoneidad y atentos a los protocolos que están marcados si estos se atienen también a los principios de

pensamos que la policía también está sujeta al control democrático poliziak baditu

y esto que comenzó con una polémica de verano hay cosas que

que creo que todos condenamos y todos rechazamos nos sorprendieron determinadas declaraciones de algunos dirigentes y estamos en un debate político ustedes han traído una pnl no una declaración institucional que probablemente igual

acordado como le he dicho en el pasillo hace una hora se hablaba lo dijo por ejemplo también

ahora de algo organizado que podía haber algo organizado detrás de todos estos acontecimientos dónde están las pruebas dónde están las detenciones que indiquen que este tipo de altercados son organizados el propio consejero en una entrevista telefónica más adelante tuvo que negar que no había ninguna relación un lunes por la mañana

que encontrase entre todos los detenidos con ninguna

política a nosotros nos sorprende mucho que siga a estas alturas diciendo que hay una estructura detrás de unos altercados de orden público

al mismo tiempo que son espontáneos son de carácter totalmente irracional usted

barrio una especie de conspiración detrás de este asunto no sé si tiene que ver algo con

por parte del gobierno se dijo en algún momento no pensamos que ninguna de estas afirmaciones son una buena estrategia para abordar este fenómeno en este fenómeno de violencia

una intencionalidad política no existe una organización ni una dirección

ante las actuaciones policiales y no compartimos señor barrio las afirmaciones que ha hecho aquí me parecen bastantes irresponsables para su propia historia para la propia historia de su formación política mezclando cosas que no tienen nada que ver y hacen un flaco favor

ha sufrido en este país con muchísimas vulneraciones de los derechos humanos ante este tema nos preocupa ciertamente la incapacidad de las fuerzas políticas que han suscrito esta iniciativa y del propio gobierno para intentar pensar y analizar comprender contextualizar y solucionar

altercados de los botellones de los litros creemos que el ejecutivo y en primer lugar el departamento de seguridad

izquierda hacer que se cumplan los protocolos policiales en lugar de tirar a dar dar seguridad prevenir trabajar con la juventud que tiene muy poco que ver con unas declaraciones totalmente irresponsables que hizo ayer

vamos a sancionar sin piedad ese es el mensaje de verdad que el partido nacionalista vasco

creo que están totalmente equivocados el a por ellos ese es el mensaje que está recibiendo la gente joven en lugar de trabajar con la gente joven para acabar con este problema un punitivismo populista que nos recuerda la peor época del alcalde azkuna

de euskadi y que además va en contra del pacto de seguridad del ayuntamiento de bilbao suscrito por todas las fuerzas políticas del ayuntamiento de bilbao nolanahi ere

altura de miras por eso nuestro tercer punto pensamos que hay que abordar el fenómeno

desde un punto de vista sociológico desde un punto de vista psicológico desde un punto de vista que haga especial incidencia también en la salud mental de la juventud en euskadi tan golpeada por la pandemia y tan golpeada por la precariedad estructural que está viviendo

joven nos preocupa que el único mensaje que reciban ahora mismo por parte de dirigentes del partido nacionalista vasco es vamos a sancionar sin piedad nos preocupa nos preocupa que no se busque que no se reflexione que no se analice los problemas que tiene el modelo de ocio que tenemos en estos momentos en euskadi del que todos

también tiene su parte de responsabilidad un modelo de ocio que no entiende el ocio

de forma masiva creemos de forma honesta que si no abordamos la raíz del problema de esta forma no vamos a llegar a ninguna solución

navarra suma ha creado una mesa con el gobierno con representantes de la juventud con la policía con hosteleros y con vecinos

aquí la única solución que hemos visto vamos a incrementar los controles policiales y vamos a reaccionar sin piedad a la gente

esa mesa ni conozco todos los detalles de esa mesa pero algo así podrían haber acordado entre los tres partidos y ahí habríamos entrado a negociar y a hablar y a dialogar con la gente joven con los vecinos con los hosteleros con la propia policía para abordar este problema

para sancionar los botellones o los litros en la calle a mí nos hacía cierta gracia no hasta los veinticinco van a ser trabajos comunitarios un chaval precario hasta los veinticinco va a hacer trabajo comunitario

precario con veintiséis años va a tener que pagar una multa tenemos dudas legales pero también políticas y éticas a través

prekarietatearen kontrako neurriak un veinte por ciento de paro

en euskadi reflexionar sobre ese modelo de ocio y ese modelo de socialización yo pregunto los problemas de los litros en el parque de doña casilda

joven que dejan suciedad no son similares a los problemas de los litros de la gente de distintas edades que deja suciedad financiada con dinero público por todos y por todas en la feria de santo tomás en el arenal

en la calle ledesma no son lo mismo no es el mismo problema el problema de los litros y del consumo masivo de alcohol no es el mismo que sacar

de hipocresía más de pensar de reflexionar de dialogar de acordar medidas en positivo para cambiar la realidad porque señor barrio y señores parlamentarios

condenar la realidad si no aspiramos a transformarla no sé para qué están ustedes en este parlamento condenar la realidad la podemos condenar todos

considero que es importante el acto que estamos haciendo hoy este debate a través de una proposición no de ley porque

fundamentalmente la primera para que las instituciones se manifiesten en este caso el parlamento vasco en contra de la violencia sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de interpretación

en el desempeño de sus tareas y ante las situaciones que ha tenido que vivir y que soportar y que son absolutamente irracionales e injustas y por lo tanto merecen

un reconocimiento que a la vez va también y una solidaridad que se expresa también a las personas que han tenido que sufrir esta violencia estos episodios de violencia en muchos casos y que han sufrido

saqueos perturbación de su vida en sus domicilios y en las calles y que por lo tanto merecen de toda la solidaridad la violencia no tiene ni categorías ni justificaciones

condenar la violencia encontrará categorías y encontrará justificaciones y propondrá debates sobre los debates para no ser claro en la condena de esa violencia la violencia que ha sucedido

ciudades y pueblos del país vasco como ha señalado el señor barrio no es una violencia que tenga que ver con los jóvenes

es más quienes han actuado allí son una minoría

como puede ser en este caso entre ellos el segmento de los jóvenes de hecho

no se habla de jóvenes se habla de personas de personas que practican la violencia porque no son los jóvenes los que

que pueden tener una edad pueden tener otra pero son personas las que practican la violencia no tiene que ver esa violencia tampoco

y en fin quién esté por hacerlo que lo haga que vaya poniendo cosas encima la mesa porque nos vamos a encontrar con una sociedad

en torno a un predicamento que poco tiene que ver con su comportamiento y por tanto vamos a entrar

contradicciones y de cinismo sobre nuestras prácticas que va a ser precioso de ver me gustará ver aquí a quienes quieran debatirlo pondré solo un ejemplo el alcohol es un problema

esto lo décimos en un país donde a un tipo de alcohol que es importantísimo para la economía e incluso para la diversión

bueno vamos a ver cómo explicamos a los que queremos educarles esto del modelo de ocio en relación con los comportamientos y con las contradicciones que nos meten en la política y en otras cosas pero en fin este es otro asunto porque mi línea argumental no va por las justificaciones y no va

clara y rotunda condenar la violencia y ayudar a la policía vasca

y eso tampoco va con las apelaciones que también se han hecho en alguna ocasión con la ignorancia los violentos son plenamente conscientes

de pensamiento y de voluntad para delinquir que lo expresan en esos actos de violencia

son personas que están capacitadas para la violencia y por tanto tienen que estar capacitadas para asumir las responsabilidades y para que no

en ningún otro grado de tibieza como decía los actos de violencia tienen que ver con sin ningún lugar a dudas el que se quiera poner una venda en los ojos que se la ponga

con una violencia organizada y las tácticas empleadas en el uso de la violencia

un componente de violencia organizada hay provocadores profesionales violentos en algunas de esas acciones

o una violencia de delincuentes que

y es evidente que también a ella se suma en algunos momentos

ese un nivel mayor de espontaneidad porque bueno pues ya que estamos aquí

haciendo algunas cosas más efectivamente es una violencia que tiene distintos distintas raíces

un componente de organización que busca perturbar la convivencia que busca desestabilizar que busca acentuar la crítica al modelo policial

que busca provocar para que ciertos pensamientos o actitudes radicales puedan tener más justificación o más influencia o presencia en el mundo en el que vivimos por lo tanto la violencia que hemos padecido tiene que tener una condena explícita tiene que tener una condena sin ningún tipo de tibieza y sin ningún tipo de categorización por eso

que contiene la enmienda transaccional que hemos realizado

pues hablaremos de otras cosas pero ciertamente cuando se ha producido una violencia gratuita innecesaria

solo por el hecho de practicar la violencia querer aplicarle a eso atenuantes en relación al modelo de ocio a las dificultades sociolaborales que puedan tener determinados colectivos

que tiene una sociedad es simplemente querer escaparse de una condena unitaria

la mayoría de la sociedad vasca está observando con rigor y con responsabilidad las medidas que las autoridades sanitarias han venido implementando para combatir la pandemia

hábitos deseos en el cumplimiento de esas medidas pero no es menos cierto que algunos y algunas han tenido comportamientos contrarios

han sido y son conductas irresponsables incívicas

nuestro grupo condena condenamos rotundamente udan zehar eta kasu batzuetan

ez den fenomeno batean molestias a los vecinos destrozos en propiedades privadas en negocios daños en el mobiliario público

son algunas de las consecuencias de estos comportamientos algo muy grave sin duda que condenamos y rechazamos sin ningún de duda lo más grave es que unos pocos no pueden poner en riesgo

para dejar atrás esta pandemia no son mayoría pero sí que ponen en riesgo la salud de la mayoría no podemos olvidar a todas las personas fallecidas a quienes han enfermado a quienes luchan a día de hoy por recuperarse

que parece hacer como si nada hubiese pasado nada hubiese estado pasando y como sin ningún sacrificio hubiese tenido que hacer esta sociedad decía la consejera de sanidad gotzone sagardui esta misma semana ante la comisión de salud y casi estamos bien pero no podemos relajarnos en los minutos de descuento también se pueden perder los partidos y desbaratar todos los esfuerzos realizados anteriormente ni relajación ni justificación ni un cierto grado de condescendencia o un atisbo de justificación ante estos hechos

sí sancionar sin piedad cuál es su alternativa

ha hablado de que la policía tiene que actuar con mano izquierda qué entiende usted

qué alternativas da qué tiene que hacer la policía esperar a que se les pase esperar a que dejen de estar como el eje de la tierra acompañarles después a casa

pero en esas circunstancias usted debería saber que no es precisamente labor sencilla ni tarea fácil

por lo tanto ni relajación ni justificación ni condescendencia nuestra policía cuenta con todo nuestro apoyo y respaldo en la difícil labor

están llevando a cabo un trabajo profesional para protegernos mejor a todos y a todas gure poliziak

lan sailean denok hobeto babesteko lan profesionala egiten ari da es evidente que se están articulando medidas preventivas para que situaciones como las descritas

no vuelvan a repetirse medidas sobre todo preventivas que impidan su reproducción pero tampoco queremos pecar de ingenuos es cierto que esto es un problema que va más allá de lo policial francamente no creemos que exista ninguna medida mágica una única solución

evidentemente la actuación policial es y será necesaria cuando así lo requiera la situación pero si me permiten la expresión

todos y todas las instituciones por supuesto pero el esfuerzo debe de ser necesariamente colectivo

estos comportamientos responsabilidad responsabilidad y responsabilidad besterik ez

gracias señora presidenta buenos días de nuevo a todos

porque jamás nos mordemos la lengua vox rechaza frontalmente cualquier manifestación violenta venga de donde venga

absolutamente injustificables de las que son responsables principales quienes las provocaban

en consecuencia vaya por delante la condena de vox de mi grupo ante este tipo de incidentes sin adjetivos sin ningún tipo de paliativo no comparto vox no comparte esta tendencia tan excesiva de echar balones fuera de tratar al prójimo

propia de sacudirse la culpa aludiendo a modelos sociales y a modelos de ocio como la causa primigenia de la violencia en las calles hace algunas semanas después de muchos meses de pandemia el gobierno vasco a través de su presidente y de sus consejeros de seguridad y salud

advirtió que vigilaría las convocatorias de este tipo de reuniones con resultados francamente desalentadores como hemos podido comprobar

también porque los botellones jamás han sido legales tampoco lo eran antes de desatarse la crisis sanitaria aún en curso y se ha permitido hacer sin rubor

y sería preciso hacerlo si hablamos de las actuaciones policiales ante estas concentraciones que han terminado como el rosario de la aurora no voy a poner en tela de juicio la actuación concreta de los agentes de la ertzaintza y de la policía local y municipal pero sí

enviando a agentes casi indefensos ante multitudes imposibles de controlar falta de previsión decisiones francamente mejorables y descoordinación evidente de hecho se han sucedido las críticas en este sentido también relativas a la escasa dotación de efectivos para enfrentar

y producidos los incidentes escasez de denuncias poquísimas sanciones algo que anima a los jóvenes y no tan jóvenes violentos a mantener su actitud

por todo ello consideramos que apoyar a nuestros agentes es francamente insuficiente

de este tipo para evitarlas si fuera preciso para garantizar la seguridad de los agentes a los que se obligue a intervenir cuando se producen los incidentes estos días se está hablando mucho de esta cuestión hemos oído al alcalde de bilbao palabras gruesas para con los jóvenes

en vox defendemos la previsión adelantarse a problemas que se sabe que se producirán y sabiendo lo que iba a ocurrir lo que se estaba preparando en las concentraciones en cuestión no es de recibo enviar dotaciones insuficientes de ertzaintza y policías locales

dicho esto apoyar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad por supuesto que sí rotundamente sí desde vox condenamos repito nuevamente estos actos violentos de forma rotunda pero creemos que es necesario condenar apoyar y hacer y esto último es lo que no vemos recogido en la transaccional que aparece

en la propuesta inicial del grupo ciudadanos en su punto dos en el cual se decía que se instaba a las instituciones y al gobierno vasco a que adopten las medidas oportunas

no se repitan en nuestras calles y plazas creemos que era un punto importante y que no entendemos el porqué se ha eliminado en este tipo de transaccional muchas gracias

posizio sinplista bezain manikeo batekin ekarri da una posición simplista porque vemos que nadie tiene una

de los disturbios que se generan a partir de ellos y de la actuación

y no sirve un discurso fácil para dar solución a una realidad que es compleja y que está superando también a quienes deben adoptar soluciones y un discurso maniqueo porque ustedes se han erigido como un nuevo tribunal de la santísima inquisición

son malos malísimos mientras que otros son buenos buenísimos se establece categóricamente que los jóvenes el colectivo son enemigos de la sociedad deben de ser condenados sin revisión posible deben de ser arrojados

al puro estilo dantesco sin ninguna esperanza además de retorno

existen los héroes la policía que merece todo el aplauso y reconocimiento por su actuación siempre ecuánime

ninguna justificación tolerancia cero se exprese con la palabra que se exprese y dicho esto cuál es la solución

enviar a la policía cuánta cómo efectivamente decía aburto sin piedad hacer qué más represión más madera más efectivos

es suficiente se movilizarán todos necesitamos más señor atutxa sin piedad tiene orden de no intervenir la ertzaintza

enfrente de ellos se está produciendo un fenómeno que viene sancionado por la ley

porque se evitan males mayores para evitar ese es el debate pero aburto dice sin piedad sin piedad no interviene la ertzaintza pero debe de hacerlo la udaltzaingoa se va a hablar sobre la descoordinación que se produce

ahora en bilbao y nos proponen aplaudir la actuación policial toda debemos de dar por buena el tirar a dar en donostia que dejó

o damos por buena la actitud policial absolutamente permisiva que unas semanas unos días después pudimos ver en pozas donde no se interviene ante destrozos

de qué depende una actuación o la otra de la presunta paternidad política

están actuando dependiendo presuntamente próximos a no sé quién estamos convencidos dice el señor barrio a qué parte de paternidad política achaca usted

les consta nada a ustedes les interesa airear una mentira una patraña construir una mentira ya negada por quien podría además saber algo que es el señor erkoreka ustedes se posicionan a favor de comerciantes y hosteleros nosotros también hablamos con ellos en donostia precisamente donde ocurrieron los hechos vandálicos

pero también por su futuro no solamente por los hechos vandálicos y vimos a hosteleros que protestaban por la afección de las medidas anticovid en sus negocios cómo fueron recibidos a porrazos por la ertzaintza en la plaza de la constitución también tenemos que aplaudir esos hechos

que se autolesione y denunció un trato degradante y humillante tenemos que aplaudir también estos hechos al menos tres casos por actuación con perfil racista durante la pandemia por parte de la ertzaintza aplaudimos estos hechos

cinco reconocidos por el propio departamento las amparamos las justificamos las aplaudimos se investigarán hasta la última consecuencia

que denuncian precariedad o contra trabajadores que protestan por la depauperación de sus puestos de trabajo también algo

de pandemia aplausos a críticos a todas estas actuaciones policiales respaldo a toda su labor pues yo me niego señorías

en blanco erantzun poliziala gainera

gracias presidenta a mí sí me parece una solución condenar la violencia y

a mí me parece una solución a mí me parecería un fracaso no hacerlo mi obligación es soluciones

fracasos mire señor martínez que le vuelvo a agradecer además aunque me ha criticado yo creo que injustamente le vuelvo a agradecer su enmienda que yo creo que planteaba debates interesantes pero ha querido desviar un poco la atención aquí dice en la pnl la juventud

actitudes insolidarias de personas que perturban la confianza ciudadana incumpliendo personas lo redacté yo

que no nos podíamos meter en otra cosa que no fuera personas responsables fuesen jóvenes o no

a la juventud yo eso no se lo tengo que explicar me ha escuchado usted fatal

jóvenes radicales no son la juventud o algunos jóvenes manipuladores no son la juventud o algunos jóvenes violentos no son la juventud señor martínez está bien claro que usted no

manipulando un poco lo que yo trato de traer yo hablo con muchos jóvenes

contacto con muchos jóvenes porque trabajo tengo hijos jóvenes que el señor díez les conoce

mi entorno y la juventud saben de verdad lo que quiere

y no quiere enfrentarse a la policía al revés

a la policía y yo no exagero cuando hablo de la marca de la izquierda

el enfrentamiento con la policía con la autoridad sistemática en todos los sitios no es una estrategia pandillera o de botellón no es una estrategia

que subyace de todo esto eso está bien claro mire ayer precisamente tuvimos mi grupo mi partido

reivindicar el papel de los jóvenes de los jóvenes esos que respetan que igual a alguno de aquí no le gusta pero de esos

ideas políticas desde luego sabemos que son conductas de radicales que sean jóvenes o no y nosotros lo que avalamos y lo que respetamos y lo que queremos es valorar esas conductas de jóvenes como los que yo conozco en su inmensa mayoría

señora martínez hay que transaccionar y acordar y lógicamente yo tenía un punto que me gustaba mucho más que el de la transacción pero yo he tenido que acordar

que podemos hablar de insuficiencias o podemos hablar de desbordamientos o de falta

el día de las soluciones era condenar los actos y apoyar a la ertzaintza desde luego me daba las gracias

pero una vez más y como siempre no lo que ha hecho es perder una oportunidad cada vez que sale a hablar de estos temas señor arzuaga usted y su grupo pierden una

cada vez más solos en relación con condenar los actos de violencia condenar las actitudes de agresión

sería mejor noticia que ustedes se sumasen a la mayoría algún día de estos pero bueno una vez más

siguen perdiendo los trenes y en este caso uno más en relación con esta cuestión disfrácelo

iniciativas al final me dan las gracias pero lo que sientan es

y está claro que tiene que distraer en relación con lo que

había críticas a los actos violentos cuando se denunciaban esos actos violentos

en ese sentido fue muy claro cuando dijo las situaciones estas son el neoliberalismo

existencialista eso es lo que habría que analizar y no precisamente los actos de violencia condenarlos desmarcarse de esos

ustedes siguen perdiendo trenes ustedes siguen perdiendo oportunidades

esperemos que cambie y nosotros seguiremos trayendo desde luego estas iniciativas a cabo señor arzuaga ertzainas heridos agredidos insultados

no es la marca del liberalismo democrático ni la de las ganas de diversión y esas actitudes

han descrito una verdad y la verdad es importante tan importante como la puntualidad lo que pasa es que después de eso

pues vamos a aprobar una declaración de condena en nuestro sentido insuficiente

esas son las conclusiones de este debate le he dicho en la negociación señor barrio que podía haber sido una declaración institucional y podríamos haber aprobado

le proponíamos introducir dos asuntos que ustedes se han negado uno

con atendiendo a los criterios de proporcionalidad y de idoneidad

que usted sabe perfectamente igual que yo que es el modelo de ocio y la situación en la que estamos viviendo en la calle también se han negado a hacerlo nosotros no tenemos la solución mágica para terminar con todo eso

de hablar desde una condena a la violencia desde un respaldo a la policía si hace el trabajo como lo tiene que hacer de un tercer tema que está intrínsecamente relacionado con eso que es el modelo de ocio que tiene el conjunto de la sociedad y especialmente la juventud heredado por cierto

por sus mayores y señor prieto contradicciones todas

creo que tener contradicciones es bueno se trata de gestionarlas y de llegar a acuerdos este no es un debate ahora la ley de juventud donde hay un apartado especialmente dedicado al tema del ocio vamos a abordarlo yo les animo al resto de grupos también a abordarlo y señor atutxa sin piedad ha repetido usted

cuando amenaza con dejar de hacer inversiones porque un gobierno de izquierdas toma medidas para abaratar el recibo de la luz sin piedad ojalá arantza tapia que hoy no está aquí le mire a los ojos a iberdrola y le diga sin piedad

la piedad en un sentido religioso es sentir compasión hacia alguien que merece un castigo puede ser que

necesiten no que puedan ser sancionados porque han cometido un acto

del estado de derecho y alternativas le he dado algunas y vuelvo a repetir no tenemos la solución ni la alternativa mágica por ejemplo

policía con el conjunto de la sociedad y buscar acuerdos y medidas comunes nos parece un buen primer paso y vuelvo a decir condenar la realidad está muy bien todos lo hacemos pero si no damos pasos para transformar esa realidad para buscar una sociedad mejor

yo soy de los que opina que es muy útil haber traído lo que hemos traído aquí y además haberlo circunscrito

el rechazo a la violencia a la condena la violencia y

con la policía vasca porque efectivamente hemos ido viendo a través de las distintas intervenciones

eso más o menos se puede aceptar siempre que se ponga una sombra de duda sobre la actuación policial y entonces que a un colectivo

si es que ha habido en algún momento algún exceso que obviamente deberá de tener su tratamiento o lo que se plantea

pero es que tenemos un modelo de ocio que es malo es que tenemos un modelo de relaciones laborales que es malo es que tenemos

sectoriales que también afectan a la vida de las personas y que pueden generar tensiones que deriven en violencia que es lo que se viene a plantear en alguna intervención

ciertamente hemos querido evitar eso hemos querido evitar que en el resultado final aparecieran

o aparecieran elementos de poner en cuestión determinados modelos sectoriales para que tanto la condena a la violencia

estuviera de alguna forma condicionada y no fuese tan clara o tan rotunda como es la voluntad por lo menos de los grupos políticos que hemos suscrito esa enmienda y efectivamente creo que hemos cumplido con lo que

que es que hoy en el parlamento hubiera un acto que no estuviera trufado por la tibieza

por la justificación peregrina sino que fuese claro y nítido

de apoyo a la labor del colectivo de la
policía vasca muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

señor martínez nos han pedido desde su grupo reflexión y análisis es necesario y es necesario seguir haciéndolo y desde el ámbito de nuestras instituciones

se viene trabajando desde hace años con diversas iniciativas para atajar

de este tipo de actos de botellones de consumo de alcohol en nuestras calles trabajos iniciativas que en la mayor parte de los casos la propia pandemia ha podido ralentizar pero desde luego no están olvidados ni están

en un cajón estamos dispuestos a trabajar con ustedes y con el resto de los grupos de esta cámara seguir profundizando en qué posibilidades qué políticas podemos diseñar en ese orden

con respecto a la compasión y

puedo tener muchas virtudes que me adornen pero otras desde luego carezco de ellas

por qué le digo esto a ver no podemos quedarnos en medias tintas

lanzar el mensaje de tranquilos que no os va a pasar nada no no puede ser no debe de ser así

muy irresponsable y desde luego como parlamentarios y parlamentarias en ningún caso ese debe ser el papel que debemos de adoptar finalizo

insistiendo en el contenido de la transaccional firmada condenamos los hechos y los ataques producidos y desde luego damos nuestro

a toda la policía vasca que lleva muchos meses implicada en preservar la salud de todos y de todas eskerrik asko eskerrik asko atutxa jauna

condenar apoyar y hacer fundamentalmente hacer necesitamos actuaciones concretas e ir más allá de las palabras y las condenas que por supuesto compartimos como no podía ser de otra manera algunos grupos hablan de proporcionalidad actuar con proporcionalidad

yo me pregunto cuál es la proporcionalidad en este caso qué deberían de haber hecho actuar de la misma manera tirando piedras

es curioso el doble juego de algún grupo o algunos grupos parlamentarios de esta cámara defensores de los jóvenes pero instigadores de la violencia rechazar con la boca pequeña pero no condenar defensores de los derechos humanos pero no de los derechos y el necesario

apoyo a los jóvenes pero eso sí siempre dependiendo de la ideología que tengan creemos que el apoyo mayoritario que va a haber hoy a esta iniciativa es algo muy positivo
para toda nuestra sociedad vasca y por supuesto nosotros también lo vamos a apoyar gracias eskerrik asko martínez andrea eh bilduren ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

jauna señorías cabe la posibilidad aunque sea a título de mera hipótesis de que haya jóvenes que participen en quedadas multitudinarias y merezcan nuestro aplauso porque tienen actitudes cívicas y solidarias y en el otro lado

que merezcan nuestra reprobación no condena nuestra reprobación porque como mera hipótesis digo porque están

cabe como mera hipótesis el hecho de que haya ertzainas los cuales

orden fuera de proporción y sin embargo aquí se condena a uno sin paliativos y se les aplaude a los otros sin lugar a la crítica

no me parece mal que empleen ustedes un término concreto lo acepto me parece legítimo que lo quieren expresar así yo solo reclamo el mismo trato si prefiero utilizar otro en nombre de la libertad de la democracia y tal vez de la pluralidad les quiero preguntar me puedo expresar yo

adecuado con los términos con las palabras que sean mías y con las que me parezcan oportunas

ética vislumbro cierto autoritarismo o cierto sectarismo y porque no hay ningún tipo de obligación moral o de imperativo ético

como ustedes lo hacen tengo derecho a discrepar dice el señor barrio que pierdo una oportunidad de expresarme como ustedes lo hacen

si me expreso como el pp si me expreso como el psoe si me expreso como el pnv me convierto en el pp en el pnv y entenderán el escrúpulo que esto me genera

mezclar deliberadamente elementos anteriores elementos actuales como coartada para no asumir ninguna responsabilidad lo hemos visto en otras ocasiones condenarlo todo para no responsabilizarse absolutamente de nada

honi irtenbideak emateko y efectivamente había posibilidad para acuerdo y había posibilidades para acuerdos como en algunas localidades ya se han dado

en bakio y hoy a la tarde creo que se va a llegar a un acuerdo en galdakao sobre el término de

reprobando los ataques que se han producido así como aplaudiendo la reacción mayoritariamente solidaria y responsable de la ciudadanía no sé tiene que ver que estemos eh bildu en el gobierno en estos pueblos para poder llegar a acuerdos y que aquí

de la realidad que atañe a cada uno

no tienen autoridad o parece que no tienen autoridad hacia la policía hacia las instituciones hacía eh bildu creen que tendrá

algún tipo de impacto creen que están todos los jóvenes

temblando ante la decisión que hoy ustedes han adoptado aumenta su apego hacia la institución criminalizarles introduce en ellos valores sirve para algo es efectivo para algo y no porque ese no es

el interés es estigmatizar a la juventud por interés político y otra vez mirando al pasado añorando esquemas que ya son conocidos alguien lo denominábamos korra borroka y en una entrevista

en algunos conflictos laborales aquí lo tienen los jóvenes tras los botellones practican la kale borroka y los y las trabajadores en lucha son de eta

sino para aplicar recetas ya conocidas en este país que pasan por la represión

más sufrimiento y esto es peligroso y es perverso porque el pp también está de campaña señores del psoe y señores del pnv y está de campaña

se genera el virus el odio o contra el consejo vasco de la juventud y con esto voy a terminar

dice la redacción de los comunicados no deben de hacerse desde el lenguaje de odio ni caer en los conceptos con connotaciones peyorativas o partidistas condenar arrepentimiento

que incidan en los porqués del problema intenten humanizarlo

convivido con la responsabilidad enfocada en la no repetición no sé si por las presiones recibidas al final acabarán cambiando este protocolo solo

hartzeko esaten zuen somos de verdad un país de acogida en euskadi son ochenta y cinco agrupados en dieciocho familias las principales instituciones han ofrecido ayuda haciendo honor a nuestra autopercepción de tierra de refugio acogemos sí

mil obstáculos esas mismas instituciones acogedoras les niegan el acceso a su empleo eta bukatzeko egoerari

a las tierras escocesas del sahara después de kilómetros recorridos por mar y tierra baina ez da fikzioa

gracias señora presidenta señorías la propuesta que

a solicitar al gobierno a que presente un proyecto de ley a este parlamento que excepcione el requisito de la nacionalidad para el acceso al empleo público de personas de terceros países que así sería técnicamente como se denominaría la cuestión

lo que pasa es que yo a la luz de la intervención de la señora ubera me he perdido un poco porque

realizar consideraciones de interés sobre el tema de inmigración sobre digamos el marco competencial también del país vasco y cuestiones ya un poco más culturales o de una determinada lectura histórica etcétera

lo que es la propuesta en sí misma es una propuesta creo yo de solicitud del gobierno al gobierno precisamente de que

un proyecto de ley que excepcione esa limitación que en principio establece el acceso al empleo público en españa

una reflexión compartida que es un reconocimiento descriptivo del ordenamiento jurídico español en los

suelen ser particularmente limitativos sobre todo los del continente por tradición histórica a la hora de permitir que personas de terceros estados accedan a puestos de empleo público es una excepción o venía siendo una excepción europa el caso del reino unido por ejemplo donde

mentalidad quizá y otra naturaleza es fácil entrar y es fácil salir o que te salgan

que se permita la contratación de algunos extranjeros en los servicios de exteriores y de los gabinetes de los cancilleres etcétera en españa es cierto que es complicado esto se podría explicar como la teoría de los círculos concéntricos es decir tú para poder optar a todo el empleo público tienes que ser español nacional residente etcétera luego

europeos miembros de estados miembros de la unión europea luego estarían que esos tienen una pequeña limitación aunque poco a poco se les va equiparando tienen una pequeña limitación que es la relativa

progresivamente esto se va limitando pero es una limitación en tercer lugar hay estados los que españa en este caso tienen un acuerdo internacional o bien directamente o bien a través de la unión europea que es lo más habitual para

la juventud de la que antes se ha hablado o por lo menos la que le gustaba el fútbol

señorías para contextualizar el tema del acceso al empleo público

lo que pasa que la legislación del ebep del estatuto básico del empleado público sí que recoge una excepción que permite efectivamente

esa cuestión y permitir que se contraten personas de terceros países que sería la cuestión es que este tipo de leyes hasta ahora es inédita no se ha producido vamos he llamado a algún ministerio a algún experto

de la pandemia ha habido un caso recientemente pero aprobar una ley expresamente en cortes o en parlamentos autonómicos hasta ahora no se ha hecho

la contextualización del tema en mi opinión cuál es

en el empleo público en la contratación etcétera aquí hay dos cuestiones

y a continuación sería también cuál es la situación también que tenemos pero sobre todo

si para nosotros el empleo público consiste en una vía de emplear de reducir el paro a través de empleos que pueden ser más o menos

más o menos complicados que exigen titulaciones más o menos complejas

otro tipo de estados en esos sistemas en esos sistemas

vamos el estado se convierte en el primer empleador y además ahí

si entendemos que el empleo público es otra cosa debe tener una tendencia a la mayor especialización al mayor valor añadido y sobre todo ir reduciendo progresivamente ciertos puestos en la administración pública

que se puedan ejercer a través de sistemas de contratación pública licitaciones por las cuales se contrata a empresas privadas para que presten ese servicio entonces tenemos un modelo totalmente distinto una administración mucho más especializada cuyos funcionarios por así decirlo se dedican a un

en la ley de empleo público que el gobierno ya ha enviado y es importante creo yo

si queremos una administración más flexible y más dedicada al máximo valor añadido que pueda aportar

en caso de duda no optar por la función pública sino que si hay puestos de trabajo que se pueden ofertar desde el sector privado a través de días de contratación pública que están controladas

lo que los estudios de la ocde y lo que en los países avanzados se está

o no hay funcionarios suficientemente capacitados en número etcétera

a contratar expertos para que gestionen los fondos europeos el verdadero

efectiva falta de movilidad que existe en la función pública española en general es el tema de los requisitos

que existen en algunas comunidades autónomas que es nuestro caso por ejemplo señorías es el caso por ejemplo que también sucede

por eso nuestra enmienda que en principio lo que hace también es que el gobierno envíe un proyecto de ley con un principio básico que es la apertura efectivamente

pueda optar a estos puestos y sobre todo no discriminando por el hecho de que falte el conocimiento del idioma propio en este caso del idioma cooficial que podría ser el euskera

en las comunidades autónomas y creo que nos sucede muchas veces en euskadi

nos sucede que cierto tipo de puestos de trabajo muy especializados en ese tipo de puestos a veces no optan los que podrían ser los mejores por qué porque los r cuatro que están en la especialización como ustedes saben los médicos residentes de tercero y cuarto año

meterse en un equipo de investigación en preparar la tesis doctoral etcétera se centran en aprender euskera porque saben que va a ser un requisito que se les va a exigir

o bien la forma de calcular los puntos te hace que te cueste lo mismo que te valga lo mismo tener un doctorado

es el verdadero problema de la administración pública en general y es el verdadero problema en este caso

ha hecho el grupo parlamentario bildu bueno en nuestra opinión es incompleta no recoge el principal problema que es este del idioma porque tú puedes permitir ahora se podría aprobar una ley

cuando se apruebe la ley de empleo público el gobierno aprobará ejecutará y aplicará la ley de empleo público bien lógico eso es lo que tiene que pasar siempre pero tampoco creo yo que hay una aportación ahí de fondo sobre lo que va a ser el contenido final pero claro

bien dentro de un tiempo o bien el parlamento perdón aprueba una ley que permita y que excepcione precisamente esto y permita que personas extranjeras puedan concursar el problema va a ser que normalmente las personas extranjeras no van a conocer o no van a tener el conocimiento

y nos vamos a encontrar con la misma situación que ha pasado aquí durante mucho tiempo que es tipos de empleo interinos tal temporales esto lo otro es que no va a solucionar el problema por eso nosotros

cuya finalidad sea reclutar a las personas más cualificadas más capacitadas para el empleo público y para el servicio

es cada día más importante muchas gracias señorías eskerrik asko gordillo jauna

gracias señora presidenta voy a ser bastante breve porque creo que está bien está muy situada

voy a entrar en determinadas cuestiones que yo creo que se tergiversan a la hora de plantear el debate el acceso al empleo público se recoge dentro

concretamente dentro del artículo cincuenta y siete se habla del acceso de los nacionales

que solo por ley del estado o de comunidades autónomas se puede eximir del requisito de nacionalidad por razón de interés general

cierto que lo que serían las bolsas de contratación temporal también se rigen por este mismo sistema es verdad y yo creo que

ha habido una serie de casos mínimos pero los ha habido y es así en los que por la vía de los hechos se ha exceptuado esta actuación

hablando claramente se ha cogido todo aquello con lo que se podía contar y eso es una situación real a la que tenemos que hacer frente y esto puesto encima de la mesa

por situarlo en su contexto es una situación muy minoritaria pero que está ahí y que nos hace reflexionar bien cuál es la propuesta de fondo pues yo creo que la propuesta de fondo al final estamos todos de acuerdo regulemos

rebeka ubera nos planteaba que había la opción de traer un proyecto de ley concretamente para esto o

nuestra propuesta es otra nuestra propuesta es tenemos aquí la ley del empleo público la tenemos en este parlamento está en fase de comparecencias

de enmiendas igual le reconozco señor gordillo que he releído nuestra enmienda

pero lo que quiere decir esa enmienda si se lee dos o tres veces es que todos nosotros a través de las enmiendas acordemos qué es lo que tiene que

el gobierno no es que dicte una nueva ley o nada no no el gobierno aplicará lo que salga en ese artículo que es el setenta y dos punto cinco concretamente del proyecto de ley

se ha dado un hecho muy inusual hasta ahora en nuestra tradición

desde el grupo socialista y el grupo nacionalista vasco compartimos que si tenemos la ley de empleo público en esta casa residenciada lo lógico será que en base a las enmiendas a ese artículo setenta y dos punto cinco

valoremos cuál es la situación porque es verdad dice la señora ubera que

hay tres menciones muy concretas en la excepción pero es un punto de partida

de los grupos que sostenemos al gobierno por lo tanto creo que

un punto de coincidencia básica que tenemos que hacer frente a ello y la única pregunta es cómo

es en la ley de empleo público nada más eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

hoy entendemos que es un titular malintencionado y el titular sería este osakidetza contrató personal extracomunitario durante la pandemia y ahora ya no se le contrata debido a su origen

se le utilizó y que fíjense qué insolidarios el gobierno vasco

pero nada más esto no es para nada así no se puede poner en duda que euskadi efectivamente es un país solidario con sus instituciones

a la cabeza y el gobierno vasco en particular precisamente para evitar los populismos xenófobos y otro tipo de demagogias

el gobierno vasco promovió el que el pacto que ustedes mencionan el pacto social vasco por la migración

migratorio desde un punto de vista del pluralismo de la solidaridad y la necesidad el gobierno ha demostrado con numerosos hechos

es sensible y que tiene un compromiso firme con la integración de personas que llegan a euskadi pero es que la cuestión que hoy la casuística que hoy vemos es otra y

creo que no hay duda pero bueno un reconocimiento expreso por nuestra parte a los profesionales que dieron lo mejor de sí durante la pandemia en todos los sectores y en el sector público en particular que es el que hoy nos ocupa y desde luego esta cuestión tiene muchos matices que ustedes

no expresan en su totalidad y que son claves para analizar la situación

pandemia en el momento más grave de la pandemia en el que hacía falta personal

para hacer frente a necesidades urgentes e inaplazables y por otro lado está la cuestión jurídica

los requisitos una cuestión jurídica muy concreta de un ámbito muy concreto que son los requisitos de acceso a la función pública no es una

relación laboral cualquiera es el acceso a la función pública bien en régimen temporal o bien en régimen fijo pero es el acceso a la función pública y entre otros requisitos como pueden ser la titulación una titulación adecuada homologada

los derechos lingüísticos de esta sociedad pues está

el requisito de la nacionalidad en concreto de ser de un país miembro de la unión europea o que tenga firmados tratados internacionales la ue y ratificados por el estado español que además hable de la libre circulación de personas u otra serie de excepciones de cónyuge y demás pero ese requisito de nacionalidad está ahí y es aplicable para todas las administraciones públicas bien

temporal insisto o fijo entonces volviendo al momento momento plena pandemia estado de alarma

el real decreto cuatrocientos sesenta y tres barra dos mil veinte de catorce de marzo el que todos conocemos que declaró el estado de alarma habilitaba a las administraciones públicas y entre ellas y así

recursos humanos como pudieron ser reducir ciertas licencias permisos excedencias

para poder atender a la población para completar las plantillas de forma que en otras ocasiones había normas que limitaban esas contrataciones sin embargo para ese periodo se habilitó

las plantillas y poder dar esos servicios a la ciudadanía primero para esas contrataciones y ya estoy hablando en el caso concreto de osakidetza primero se acudió a las bolsas de trabajo

y que también esas bolsas de trabajo exigen unos requisitos como es el de la nacionalidad cuando esas bolsas cuando ya no había personal disponible en esas bolsas es decir cuando estaban agotadas se recurrió a otras formas de contratación como puede ser ya no había bolsas los currículums y en eso de currículums hubo mucha gente bueno pues que igual

y también de forma muy puntual y aislada porque tampoco se puede generalizar este hecho también algún extracomunitario pero fue una cuestión puntual que atendía a un momento muy concreto

y esos contratos no finalizaron por el origen de esas personas esos contratos finalizaron porque eran temporales y porque esas necesidades de trabajo

que el de otros muchos profesionales y desde luego no es una razón de origen es una razón de las necesidades y posibilidades de trabajo que existen en cada momento

es esa condición de nacionalidad bien si queremos cambiarla

ese guante que le da la normativa básica del estado que es el ebep como se ha dicho el gobierno vasco

recoge esa posibilidad de eximir ese requisito en unos casos concretos bien pero como decíamos

no se centren ahora en que eso es discriminatorio porque esos casos que se nombran

pero que desde luego nuestro grupo está abierto al debate y a conseguir un punto de encuentro en lo que pueden ser los supuestos más adecuados entonces ahora ya no es cuestión de osakidetza de la voluntad del gobierno vasco no no ahora ya estamos

pues uno los tiempos el agilizarlo o entorpecerlo es decir años yo no creo que podamos tardar

dependerá de la voluntad de todos nosotros y el contenido lo que digo bueno pues estamos abiertos a poder ampliar esos supuestos

a buscar o a analizar y a buscar un punto de encuentro y

no se ha utilizado a nadie han sido unos contratos de trabajo porque había unas necesidades en un momento desde luego una relación laboral con unas condiciones dignas

y por otro lado tampoco se puede poner en este momento patas arriba o intentar cuestionar todo el sistema de contratación de las administraciones públicas en general y de osakidetza en particular no se puede poner en cuestión todos los acuerdos sindicales

las bases para la contratación temporal para contratación fija de las ope de repente no podemos poner todo eso patas arriba otra cuestión es que modifiquemos la normativa que se modifique la normativa y por ejemplo usted nombraba decía bueno es que en osakidetza igual como es personal estatutario no a ver usted nombra el acuerdo de veintiuno de julio en su iniciativa en la exposición de motivos

del consejo de administración de osakidetza sobre listas de contratación temporal bueno acuerdo por cierto

y en él dice acceso el acceso se regirá por los principios de igualdad mérito capacidad y publicidad

los requisitos generales es decir los de nacionalidad los requisitos generales que se exigen para una ope y los específicos que es la titulación por lo tanto no es que a veces se exija no no es que esto es un acuerdo firmado con dos sindicatos

y siempre se hace así hasta que no se cambie bueno entonces yo

que aquí se ha intentado o que existe el riesgo de mezclar asuntos no es una cuestión de moralidad es una cuestión de legalidad fue del momento pero ahora es una cuestión de legalidad

porque es peligroso es peligroso utilizar a estas personas precisamente para intentar

que ha existido una discriminación yo creo que el camino es si entendemos que ese requisito no se ajusta a los tiempos actuales modificarlo y bueno

esa es la finalidad de la iniciativa que hoy bildu nos pone sobre la mesa no deja de ser curioso que un partido que tiene como objetivo construir una república

de serlo y rechaza todo lo que viene de fuera por ese mismo motivo hoy nos venga a hablar de discriminación por razón de origen

pero solo por motivos de origen se dejan el verdadero problema de fondo en el tintero señores

eso sí es discriminatorio y eso es lo que está ocurriendo en el país vasco pero de eso no hablan

es un lastre para el sistema vasco de salud en atención primaria no hay especialistas en medicina familiar y comunitaria una carencia que se ha puesto más aún en evidencia

y que ha obligado a contratar personal eventual para no colapsar más la sanidad en este caso de extrema urgencia entendemos que primó el mérito y la excelencia

pero este aparente sentido común que ha primado en época de pandemia debido a lo urgente de la situación

porque la realidad no lo olviden es que los médicos y enfermeras que acrediten un pe ele dos de euskera obtienen el doble de puntos que por un doctorado medio

una licenciatura eso sí es discriminatorio plantear ahora que los extranjeros de fuera de la unión europea sean contratados en función de su valía y cualificación está muy bien en vox siempre hemos defendido el mérito y la excelencia pero nos pueden explicar por qué ese mismo criterio de mérito y excelencia no se puede aplicar a la hora de seleccionar a los mejores candidatos que se presentan a una oferta de empleo público del gobierno vasco yo personalmente prefiero que me opere el mejor cirujano no el que mejor dominio tenga del euskaldun

y basada en la diversidad para defender la contratación de personas trabajadoras externas a la unión europea pero excluyen la diversidad lingüística en qué quedamos lamentablemente vuelven a ignorar el verdadero problema con el que se encuentran los profesionales que hoy quieren acceder a la bolsa de osakidetza

españoles de cuenca de sevilla o incluso del propio país vasco que se quedan fuera de nuestros centros de salud y de nuestros hospitales no porque no sean excelentes médicos no sino porque no son vascoparlantes en la actualidad esta política de euskaldunización impuesta en osakidetza que lleva a valorar el requisito del euskera por encima de la cualificación y la experiencia

y está vetando la entrada a otros tantos médicos y enfermeras de todo el territorio español y por supuesto del resto del mundo

contar con los mejores profesionales los más cualificados los mejores formados y experimentados los vascos necesitamos personal competente en medicina
no que demuestren su competencia en euskera porque esa materia es de otra disciplina eskerrik asko martínez andrea

creo que tengo la ventaja hoy al menos en este caso

sobre la señora ubera de que no se me pueda acusar de intentar buscar

con adjetivos que la señora larrauri ha puesto sobre la mesa de cara al gobierno

la iniciativa porque mi grupo cuando conoció esta situación lo que hemos hecho ha sido pedir dos comparecencias tanto en la comisión de salud en lo que tiene que ver con osakidetza

con la parte de la cuestión legal que ustedes han hablado y han puesto encima de la mesa creo que tengo esa ventaja sobre la señora ubera espero veremos lo que opinan porque desde luego mi grupo sí va a apoyar la iniciativa

por una cuestión más allá del debate de lo jurídico del que ahora hablaré pensamos que es una cuestión de justicia y creemos que al menos es una cuestión de justicia reconocer lo que ha pasado y lo que se ha hecho mal yo no busco ese titular pero es cierto que

que han trabajado para nuestra comunidad que han trabajado para lo público

y que ahora mismo no tienen esa posibilidad de trabajar para lo público y es normal porque eso afecta a la vida de estas personas es normal

haya denunciado que pase esto y por eso nos parece interesante que ese sindicato que es el que ha estado con estas personas directamente con estas trabajadoras

a explicar su visión y esto pues se ha hecho mal porque creo que se

para algo que yo creo que era positivo pero cuando no ha sido necesario

se ha utilizado la misma norma sí para que esas personas no continúen

un efecto causa exacto nadie va a decir usted no va a seguir trabajando porque es de no sé dónde desde luego mi grupo no dice que se haya hecho eso pero la práctica lo que ha pasado es que además durante la pandemia se ha entendido que estas personas eran valiosas y que podían trabajar

están en la calle y yo creo que cuando menos es de justicia reconocer

y ahora iríamos a lo jurídico a los límites

no vivimos en los mundos de yupi sabemos que existen y yo creo que la iniciativa

recoge también esta cuestión y el gobierno dice bueno vamos a verlo en la ley de empleo público muy bien

en la ley de empleo público nosotros no hemos tenido una especial urgencia sino también hubiéramos

que afectando como afecta a la vida de personas creo que también un principio es que se debería

pero sí el de que cuanto antes mejor cuanto antes mejor

hay una mayoría absoluta que incluso si no hay acuerdos la ley de empleo público

de muchos años sin salir adelante y por lo tanto si hoy hablamos de esta cosa concreta pues sí nos preocupa desde luego mi grupo va a hacer el esfuerzo

hacer el esfuerzo para que en el futuro no se puedan volver a dar

estas situaciones que tienen consecuencias sobre la vida concreta de las personas y que producen situaciones injustas que el origen de la situación injusta está en un gobierno determinado

en ese debate porque he escuchado todas las intervenciones pero lo que sí me parece importante

se ha dado sin entrar al debate de cuál es el origen o lo que produce finalmente esa situación de injusticia eso me parece en este momento importante porque me ha faltado en este debate me parece que falta el lado humano que es reconocer que haya límites legales a determinadas cosas no debería implicar incluir

desde el punto de vista de lo que podemos entender y estoy seguro que no solo el grupo que lo propone y el grupo que vamos a apoyar estoy seguro que no son los únicos grupos

que se ha producido más allá como digo del debate de cuál es el origen y sobre todo ahora de qué es lo que hay que hacer para que no se vuelva

la señora ubera hablaba de una posibilidad

una proposición de ley de lectura única también sería una reforma urgente es verdad que sería un legislar ad hoc

a veces también es una posibilidad legislar ad hoc si entendemos que el resultado es positivo aunque esté el debate de la ley de empleo público ahí nosotros

vamos a respaldar la iniciativa que se presenta y nos preocupa la situación de esas personas porque creo que todo el mundo en la calle entiende sin entrar a ese debate

que durante esta pandemia sobre todo en el sector de la sanidad también en otros pero en el sector de la sanidad

entre ellos estas personas no comunitarias y que ahora pues en este momento

de seguir trabajando cuando han estado dejándose la piel en nuestra sanidad pública y esa es una situación

del debate de los límites legales y de lo que hay que hacer ahora eskerrik asko hernández jauna

el debate que estamos teniendo al final está virando hacia

de poco sirve que una ley habilite para la contratación o para el acceso

de personas extranjeras si luego todos sabemos que el principal

estas personas no podrán acceder a un puesto permanente será porque

cuesta trabajo reconocerlo a veces en esta cámara es que el español es idioma vasco también

esto es algo que parece que nos cuesta reconocer yo he vivido

en la universidad por ejemplo hace unos años cuando todavía no habían entrado en vigor

muchas personas muy cualificadas no pudieron acceder a las universidades públicas no podían acceder a un puesto público tuvieron que quedarse en universidades privadas en aquel momento los que pudieron en fundaciones etcétera yo es que lo he vivido y luego hombre que me diga

hombre conozco como diría aquel cienes todas las personas

todas las personas que se van a londres los que se van a madrid compañeros míos de promoción que estudiaban medicina pero vamos

es que yo creo que es un poco el desconocimiento de la realidad auténtica que de euskadi y este es un debate que vamos a tener el tema del idioma a mí me parece muy bien que un señor de nacionalidad francesa

pueda optar a un puesto permanente por ejemplo en la sanidad pública vasca porque habla uno de los dos idiomas que tenemos aquí el euskera por qué no puede optar un el señor de málaga a un puesto permanente en osakidetza

y que desconozca en este caso el euskera por qué no puede hacerlo esa es señorías la gran cuestión

pero nosotros lo tendremos evidentemente y estará en la ley de empleo público que por cierto no es una ley que vaya a modernizar la administración porque ya viene

presentaremos enmiendas para mejorar el texto introducir criterios de mejora y sobre todo poner esto sobre la mesa porque esta es la situación y señorías somos una sociedad tremendamente envejecida

muy importante y si no nos lo tomamos en serio esto nos va a pasar factura

aunque voy a volver a ser breve para darle solemnidad

larrauri porque yo pensé que se iba a centrar el tema en lo que era y realmente

y le tengo que dar la razón a la señora larrauri que lo vio venir antes que yo

en esta segunda intervención se nos ha hablado de ética universal se nos ha hablado de derechos humanos diciendo

que en un momento muy determinado de la pandemia estuvo desempeñando un trabajo concreto

no por ningún origen no no es verdad pues que esto era un ataque a los derechos fundamentales y elementales se nos ha sacado el pacto por la migración

mantener en las bolsas cuando nunca han estado en esas bolsas como se le ha dicho porque no cumplían los requisitos es un ataque contra todos esos derechos humanos y la ética universal cinismo porque yo leo su iniciativa en su iniciativa usted me dice

y perfiles lingüísticos por lo tanto señora ubera

que estuvo cubriendo esos puestos cuyo origen no es nacional ni europeo

usted también los salva usted también los salva porque eso no es lo que pone en su iniciativa

por lo tanto yo no le admito que en este punto a nosotros nos recrimine ningún punto en contra de nuestra actitud

el pacto contra la discriminación ni

si hubiéramos situado esto en lo que realmente es yo ahora no tendría que ser tan duro no aquí se ha dado un hecho muy puntual muy puntual pero es verdad que es un hecho que nos ha hecho reflexionar a todos tenemos una ley en esta cámara que es casualmente la ley de empleo público vasco donde tenemos que debatir esto es que hay un artículo

que habla de esto y me dicen el gobierno y los grupos que sostienen al gobierno no quieren dar solución pero cómo que no pero cómo que no

y en este parlamento que es donde aprobamos las leyes debatimos y establecemos una solución

eso es lo que proponen los dos grupos que firmamos partido socialista y partido nacionalista vasco en la enmienda que va a salir aprobada hoy y eso es lo que va a pasar

en este segundo turno a espetarnos que casi estamos pisoteando los derechos humanos porque no es verdad

porque usted lo que defiende en esta iniciativa tiene muy poquito que ver con derechos humanos gracias eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

gipuzkoako aldizkari ofiziala veintidos de enero de dos mil veintiuno no hace tanto azpeitiko udala

requisitos condiciones de los aspirantes tener nacionalidad española

boletín oficial de bizkaia veinticinco de mayo de dos mil veintiuno de este año también

provisión como funcionario de carrera plazas de plantilla ayuntamiento de ondarroa

requisitos de los aspirantes tener nacionalidad española o de miembro de la unión europea y demás a ver usted cree que estos ayuntamientos no son solidarios

que no están de acuerdo con el pacto social para la migración que usted está diciendo

no son pueblos de acogida no tienen sensibilidad yo creo que no no o sea que están cumpliendo una legalidad como todos como todas las administraciones y hasta que no se cambie que en ello parece que estamos habrá que aplicarlo y aquí no se aplica por un tema igual de convicción

obligación legal entonces por favor

social de la migración que efectivamente el gobierno vasco impulsó pero que esta es otra cuestión que es que es una cuestión muy concreta unas condiciones de acceso al empleo público y que hay un requisito que todos sabemos y ahora ya lo tenemos tenemos prevista una modificación en la ley que aquí tenemos si es que no es que ahora lo vamos a incluir porque ustedes han traído la iniciativa es que el proyecto de ley lo tiene incluido hace mucho

lo aprobó ya el consejo de gobierno y ahora los tiempos efectivamente dependerán de nosotros de las prórrogas pidamos para presentar enmiendas

entiendo que todos pondremos voluntad y que entiendo que todos intentaremos que por fin esta legislatura

afectan a las personas a los empleados y empleadas públicas a las personas y no es verdad que en un momento que se les utilizó que no que no

que cumplían los requisitos se acudió a otras formas de contratación

y no es que qué injusto que ahora están en casa que también hay gente de las bolsas que está en casa

y esas necesidades terminaron cambiaron terminaron las posibilidades de trabajo son las que son y esas personas

que igual cumplen o no cumplen requisitos el último de la bolsa dirá que qué injusto que estoy en casa

no hay una discriminación aquí hay un cambio de posibilidad de trabajo y

elkarrekin podemos dice pues bueno ya que es una razón de personas y que es tan pues podía legislar ad hoc hombre el gobierno de españa en el que usted está está legislando ad hoc en esta materia

hombre o sea por favor no seamos seamos sensatos no bien

podemos empezar a sacar cada apartado de la ley de empleo público y legislarlo

no pida aquí lo que usted no pide allí que la legislación básica también lo puede hacer también puede usted impulsar eso de los ministerios o del gobierno del que su partido forma parte y por otro lado por último el tema de los perfiles lingüísticos bueno nosotros desde luego ahí no nos metemos este entendemos que no es el debate es un requisito más pero bueno sí que

es una cuestión de respetar derechos lingüísticos pero bueno sí que se aprecia cierta incoherencia en bildu coherencia igual en el discurso habitual

eh bildu que a veces están exigente y exquisito con esta cuestión aquí parece que se le olvida y desde luego todo lo demás es falta todos los demás tenemos falta de humanidad estamos en poder modificar ese requisito y

en el gobierno de españa en primer lugar yo soy miembro

del parlamento vasco estamos hablando de un debate que ha traído un grupo no el mío sobre una cuestión que ha ocurrido en euskadi yo desconozco seguramente existirá desconozco si en otras administraciones si en otras comunidades autónomas si en otros territorios ha sucedido lo mismo o no si se ha contratado

lo desconozco pero estoy en este parlamento y este debate está aquí y si yo tengo que decirle algo a los grupos que sostienen al gobierno y al gobierno se lo tengo que decir en base a lo que pasa aquí y además la legislación básica se ha hablado en el debate

ya recoge la posibilidad es que es un debate de aquí más allá de las diferencias que podamos tener de la valoración como le he dicho antes de

etcétera o si responde solo a la situación jurídica con los límites legales más allá de eso en este debate creo que la comunidad autónoma tiene la capacidad porque lo recoge la legislación básica de que en el futuro no se puedan volver a dar esas situaciones ustedes dicen esto ya está recogido en el proyecto de ley de empleo público vasco de acuerdo y yo le he dicho nosotros estamos dispuestos a eso

entonces si alguien propone que no ha sido mi grupo legislación ad hoc

me refiero a legislar es una cosa muy concreta claro que sí por qué no no estaba sobre la mesa porque nadie ha propuesto el trámite de urgencia se ha hablado pero han propuesto una ley sí sería una posibilidad porque igual que se podía haber hecho antes antes de la ley de empleo público es verdad

pero es posible no sería malo per se si el objetivo fuera compartido

puede ser a través de una modificación legal de una ley puede ser a través de una ley concreta por lo tanto sí se podía hacer

lo que nos están pidiendo aquí porque lo que estamos proponiendo aquí es para que lo haga el gobierno vasco porque el gobierno vasco lo pueda hacer o el parlamento vasco lo pueda hacer a través de la ley de empleo público

pero también la posibilidad de que el gobierno vasco lo impulsase que es lo que se pedía

es una posibilidad por lo tanto creo que no es cuestión de echar balones fuera sobre todo de cara a quienes no hemos entrado a eso que usted ha definido como la búsqueda de un titular para decir que ustedes han utilizado a la gente y le han dejado en la calle